este confinamiento supuso el cese total de todas las actividades supuso también cancelar toda la movilidad la respuesta de la ciudadanía fue digna de elogio la situación en estos primeros meses fue crítica por el sistema sanitario

todos ellos respondieron con un gran nivel de compromiso profesionalidad y responsabilidad dando respuesta a las necesidades y urgencias planteadas

birusaren transmisio komunitarioa eteteko en esta segunda ola se ha logrado evitar el confinamiento domiciliario y se ha mantenido la actividad con una especial mención a la educación presencial que se ha logrado mantener gracias al esfuerzo compartido de toda la comunidad educativa

medidas restrictivas especialmente para limitar la movilidad y las relaciones sociales en paralelo y desde el día veintisiete de diciembre

la vacunación va a necesitar muchos meses para llegar al conjunto de la sociedad y parece que comienzan a producirse determinados retrasos en su producción y distribución disfunciones no achacables al gobierno vasco que salvo alguna descoordinación ya explicada está procediendo de un modo encomiable al complejísimo proceso de vacunación en un orden previamente protocolizado mereciendo especialmente todo el departamento de salud

por su eficaz trabajo y nuestro deseo de que continúe trabajando en su puesto sabiendo

altavoces a determinadas visiones políticas traumatizadoras y tacticistas de corto plazo lo que por cierto no ayuda al necesario sosiego social

la evolución de los contagios y las hospitalizaciones las consecuencias de la pandemia en la actividad económica y el empleo y la evolución previsible de la vacunación

oinarria da eta izango da en euskadi vamos a seguir cumpliendo la estrategia de vacunación frente a la covid diecinueve elaborada

euskadi junto a seis comunidades y las asociaciones profesionales esta estrategia se aprobó el dos de diciembre del pasado año

siguiendo las recomendaciones de la agencia europea del medicamento en relación a las vacunas existe una única estrategia para toda europa para el estado y para euskadi es la misma estrategia y está condicionada por un factor determinante la escasez por el momento cumplir las prioridades y vacunar a las personas más vulnerables y expuestas va a suponer un alivio para el sistema hospitalario y especialmente la ocupación de camas uci así como sobre todo una reducción de la mortalidad entre estos colectivos

se asienta sobre tres pilares punto de vista sanitario la estrategia general de organización asistencial

la realización de test y cribados y el plan de vigilancia control y rastreo de casos y contactos estrechos punto de vista socioeconómico

el plan bizi berri tenemos un objetivo en dos fases primero situar la tasa de incidencia acumulada en catorce días

segundo bajar esta tasa hasta los sesenta casos este es un objetivo compartido por todos los niveles institucionales por lo tanto un objetivo
de todos en euskadi en cada territorio histórico y en cada municipio eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua

quienes se han vacunado indebidamente deben asumir responsabilidades sean

y tengan el cargo que tengan pero también quienes lo han

para seguir en su cargo desde el momento en el que mintió en el parlamento

sinesgarritasun kontua da no ha respetado a las miles de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que deben de ser vacunadas cuanto antes han prevalecido los intereses personales a la preservación de la salud pública

que no nos mienta la sociedad vasca se merece un gobierno honrado y honesto un gobierno que nos diga la verdad sagardui andreak gezurra esan zuela argi geratzen da begira

que los responsables del departamento de salud y los de osakidetza no conocemos de este asunto hasta el día

cuando ha quedado demostrado que ya el quince de enero lo sabía y además la directa de osakidetza lo da por bueno dice perfecto

consejera puedo entender que les resulte más atractivo que yo lo supiera pero no no lo sabía y al día siguiente quedó claro que lo sabía

como si fueran suyas no como hacen con todo

momentos y eso merece que se gestionen con responsabilidad txertaketaren gestioarekin

la consejera ha dicho la verdad y en cualquier caso ha elevado una consulta al a comisión de ética pública informando sobre los hechos y las decisiones adoptadas el día diecinueve de enero tuvo conocimiento de dos hechos basurto por una información de un sindicato a un medio de comunicación

y el otro presentó su dimisión actuación rápida y contundente

la consejera informó en esta cámara con total transparencia y una semana después veintisiete de enero volvió a comparecer ha dicho la verdad rechazo las acusaciones falsas

vamos a mantener el compromiso diario en favor de la salud pública la asistencia sanitaria la vacunación y el estricto cumplimiento de las normas con total entrega

gracias presidenta egun on denoi señor consejero hoy los socialistas vascos queríamos

porque llevamos algo más de diez meses inmersos en una crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid diecinueve y el sector del turismo

gravemente se han visto afectados por la limitación de su actividad primero con un confinamiento decretado a través del decreto de alarma y luego por una serie de medidas que se estaban implantando para evitar la extensión de coronavirus como han sido los cierres perimetrales

interprovincias entre comunidades autónomas o entre países

queríamos visto además también el balance que el eustat hacía para el año dos mil veinte en el que señalaba que había habido una caída del sesenta por ciento

bien es verdad que estábamos en aquellos momentos hablando de cifras récords de visitantes en euskadi con incrementos hasta del quince por ciento en el mes de febrero un mes antes

de alarma bueno la verdad es que el tema del turismo

a partir de entonces y una caída además del número de visitas muy importante y sobre todo en el indicador de visitas internacionales que era uno de los indicadores que más en alza estaban en aquellos momentos

de turismo comercio y consumo que usted lidera desarrolló un plan de resistencia para un plan sobre todo que tenía el objetivo

del comercio y de la hostelería y que estaba dotado en aquel entonces de setenta millónes de euros hace escasos días en el consejo de gobierno se aprobó una orden de ayudas directas para el turismo vasco y

de un plan de sostenimiento del turismo en euskadi que ese plan estaba dotado con veintiuno millónes de euros y además conllevaba además de ayudas directas conllevaba

en fin queríamos conocer con más detalle consejero si es posible ese plan de sostenimiento del turismo vasco qué medidas cómo se va a materializar y qué medidas adicionales
conlleva ese plan muchísimas gracias eskerrik asko corcuera andrea

efectivamente esta pandemia mundial está afectando a muchos y diversos sectores del tejido productivo de euskadi es evidente que algunos por sus características se han visto especialmente afectados

crecía los primeros meses de dos mil veinte el tres coma dos por ciento en visitantes

los informes que emite nuestro observatorio vasco del turismo enfokatur señalan que antes de la pandemia mostraba crecimientos de empleo superiores a otros sectores de la economía porque este es un sector relevante para nuestro territorio representa más de un seis por ciento del pib

en materia de turismo de españa pero ahora en esta nueva situación lo que necesita el sector

un plan que está siendo reconocido y valorado tanto por el sector como en diferentes noticias que han salido estos días reconociendo la rápida y la contundente reacción que ha tenido

en apoyo al plan de sostenimiento y a este sector del turismo es un plan compartido hemos escuchado al sector

este plan está dotado de momento con veintiuno millónes de euros que se suman a los setenta millónes del plan de resistencia del dos mil veinte

por un lado dieciocho millónes de ayudas directas que llegan de recursos extraordinarios

a empresas de uno a tres trabajadores hasta los quince mil a empresas que superan los cuarenta y nueve trabajadores y con un incremento en el caso de las agencias de viaje unas agencias de viaje

tenían que devolver y así debe ser por normativa europea las devoluciones a los consumidores y a los usuarios pero no estaban recibiendo

por lo tanto hemos querido remarcar esta difícil situación y las ayudas que recibirán estas agencias mediadoras van a llegar hasta los veinte mil euros

por otra parte acometeremos el plan de promoción y dinamización del sector turístico dotado con tres millónes de euros del presupuesto del departamento nuestro objetivo

es preciso seguir reforzando la marca euskadi basque country para cuando se reactive la movilidad mediante campañas estacionales y de reconocimiento y con la promoción

y finalizo como bien saben además de este plan de sostenimiento del turismo el diez de diciembre

unas ayudas que quisimos que fueran ágiles y eficaces por lo que simplificamos el procedimiento administrativo y creamos un equipo de veinte personas para trabajar exclusivamente

el compromiso del departamento fue empezar a pagarlas antes del treinta y uno de diciembre y así lo hicimos

a día de hoy han sido aceptadas el sesenta por ciento de las solicitudes y más de cinco mil ya están pagadas a fecha de cuatro de febrero

vasco con esos dieciocho millónes de euros en ayudas directas también sean recibidas con celeridad en el menor tiempo posible el plazo de solicitud es hasta el veintitrés de febrero

y tenga por seguro que nuestros esfuerzos van a seguir siendo este apoyo al sector y siendo lo más ágiles para poder seguir ayudando a un sector que lo necesita y que está pasando

toda la oposición de manera unánime hemos pedido la dimisión de la consejera de salud precisamente por el escándalo de las vacunas privilegiadas considera usted que las explicaciones y la investigación realizada hasta ahora son suficientes

intención de asumir responsabilidades políticas la verdad es que nos había quedado también bastante claro que no se asumirían responsabilidades políticas cuando escuchamos

en esa mezcla habitual entre gobierno y partido decir que el debate que el tema estaba cerrado el debate se cerraba aquí y ahora y la verdad es que estamos acostumbrados

los debates pasando millas bastante del debate y también de la oposición que no quieren hablar del escándalo de las vacunas privilegiadas pues bueno estamos una semana de incidentes callejeros

las luchas sindicales a eso se le llama

y las cortinas de humo se ponen cuando no se quiere hablar de cosas que

a uno y es que en euskadi se ha vacunado ilegalmente

exconcejales de su partido político y altos cargos médicos euskadin

y es algo que también en el oasis vasco pasa en todo caso sí quiero

no vamos a dejar que se cierre en falso este asunto porque es verdad que hemos perdido la cuenta de cuánta gente se ha vacunado y de quién se ha vacunado yo estoy segura de que usted mismo no se ha vacunado nik

baten batek ere hartu duen edo ez txerto hau porque nos habla de investigaciones internas pero es que son unas investigaciones que no conocemos ni cuáles son ni cuál es su resultado

este protocolo que lleva esta mancha de agua de un medio de comunicación que es el único protocolo de vacunación que conocemos que no ha sido negado y suponemos que es válido

así de esta manera el protocolo de vacunación de euskadi pues la verdad es que no es muy normal en definitiva irregularidad y opacidad irregulartasuna eta ilunkeria

no es una manera de abordar una campaña de vacunación en una pandemia oposizioak

mire señora gorrotxategi a quien más daño está ocasionando esta situación es

por el proceder de dos directores con responsabilidad pública que debiendo haber tenido en cuenta el criterio de los colectivos priorizados

no es aceptable estas dos personas conocían los criterios de priorización y los protocolos que son públicos el primero

euskadi y las asociaciones profesionales fechado insisto el dos de diciembre y actualizado el diecisiete de diciembre y es público

decenas de miles de profesionales y cientos de ellos deben asumir con autonomía e inmediatez

responsabilidades de gestión en esta organización como en todas

no puede garantizarse que no se produzcan errores o comportamientos irregulares no hemos ocultado o negado errores o disfunciones

y espero que en su caso no sean graves no podemos garantizar que no se produzcan fallos ni que todos los procedimientos sean perfectos al contrario

sí podemos garantizar que si hay fallos habrá reacción rápida como lo ha habido clarificación transparente y si fueran situaciones graves

como ha sido los hechos acreditan que ha habido dos irregularidades graves dos que han sido detectadas clarificadas y depuradas los hechos acreditan que la reacción ha sido inmediata contundente y transparente

que reaparezca usted para hablar por fin de este tema porque a muchos vascos nos da la sensación de que el departamento de salud y la señora sagardui están en un sálvese quien pueda en medio de un caos creciente caos evidente en la campaña de vacunación plan no o al menos lo ocultan ayer mismo usted lo habrá leído la delegada del sindicato médico y médicos de emergencias decía la vacunación en euskadi es desastrosa y está mal organizada pero el descontrol no hay ya quien lo disimule tras la crisis de las vacunaciones irregulares

a la vista de las cámaras consentidas y conocidas previamente y con decenas de dosis

dimisiones en debabarrena de personas exculpadas por la consejera pero señaladas luego por su calamitosa intervención en el parlamento

rebelión de sanitarios denuncias sindicales y ojo probables actuaciones penales por parte de la fiscalía en unas semanas lamentablemente como usted dice

de ser un orgullo para nuestra sociedad al descrédito por la actuación de sus responsables políticos por eso le pregunto cómo valora la crisis del departamento de salud con la señora sagardui al frente agravada por el escándalo de las vacunaciones
irregulares y sus consecuencias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna reaparición como si no hubiera hablado de esta cuestión públicamente hasta ahora

señor iturgaiz yo creo que está sobreactuando no hay crisis ni caos en el departamento de salud y en osakidetza

tengo una altísima valoración de todas las personas que luchan a diario contra la crisis covid en el departamento de salud y en osakidetza cuentan con la confianza del lehendakari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

la hacen con lo que está pasando con las vacunaciones irregulares para además relativizar este tema como lo hace su partido político desde el pnv nos dicen que la oposición estira el chicle de las vacunaciones y usted mismo aquí nos recuerda

empañar la labor de la consejera hablemos en serio de esas decenas de vacunaciones irregulares a ver si son insignificantes por qué si eran

por qué tienen que dimitir maiz y sabas si total eran dos de cuarenta y cinco mil señor urkullu

la dirección de osakidetza a sus compañeros del pnv señor sabas según él al más puro estilo mafioso y si eran dos de cuarenta y cinco mil entonces

que no sabe nada luego que sabía pero no autorizaba y luego se manda a la televisión a grabar el show y la performance en santa marina señor usted debe actuar lehendakari y sabe que la señora consejera debería ser ya en estos momentos

es un momento crucial lehendakari la señora sagardui no ha estado a la altura

está bajo sospecha e inhabilitada para dirigir la lucha contra la pandemia

es que el plan de vacunación no existe o quizá existe más para unos que para otros quizás más para exdirigentes del partido nacionalista vasco en puestos políticos sanitarios

por lo tanto dónde queda su exigencia de ejemplaridad lehendakari a una sociedad vasca que muy mayoritariamente cumple las normas qué hay de su ejemplaridad la suya la de su gobierno

ante ese ir y venir de vacunación sin control mientras se desviaban

de verdad que usted cree que eso es lo correcto yo le estoy escuchando esta mañana y usted está en plan negacionista

porque la sociedad vasca está pidiendo responsabilidades políticas señor y usted mismo lo dijo rigor y transparencia pues bien por honestidad por rigor por transparencia por responsabilidad la señora consejera debe asumir la responsabilidad política de este caos y dimitir o ser cesada por usted

porque oye se lo digo muchos creemos que ya llega tarde

en todo caso ha hecho usted mención a la buena labor de los profesionales y yo digo buena labor de los profesionales y de los cargos con responsabilidad

y para intentar desmentir lo que usted plantea del caos de la crisis mire el departamento de salud y osakidetza siguen funcionando con normalidad en un momento de gran dificultad

de toda la atención sanitaria como por ejemplo la campaña de medio millón de vacunas de la gripe o los cribados de cáncer por citar actuaciones además de la propia

además de la atención primaria la asistencial hospitalaria que conviven con la atención al coronavirus y trabajan también en colaboración con todo el sistema sanitario vasco en su conjunto y osakidetza se gana la confianza de la ciudadanía día a día también por su planificación poniendo

detectando dos casos irregulares graves y actuando de inmediato y con toda contundencia

ganando la confianza desde marzo con sus profesionales responsables técnicos y directivos

a la lucha contra la pandemia contra un virus desconocido y con graves afecciones a la salud yo comparto comparto con la mayoría de la sociedad

y de mayor confianza social porque cuando la ciudadanía vasca entra en un centro de salud o en un hospital siente que está en buenas manos en buenas manos gracias a los profesionales y gracias a los cargos que planifican y que gestionan no hay crisis

hay una crisis provocada por un virus destructivo y global

eficiente en una lucha sin cuartel desde la planificación del departamento de salud y de osakidetza me sorprende tanta atención a una crisis que no existe

y la desconsideración por su parte de la realidad de una organización que gana así confianza de la ciudadanía vasca en unos momentos tan delicados y difíciles para la salud pública pero la gana

y a la labor de los cargos públicos con responsabilidad también para la planificación de toda esta actuación contra este virus letal y destructivo eskerrik asko

buenos días señor lehendakari la nueva legislatura comienza como ha terminado la anterior marcada por la covid diecinueve y por la realidad generada por la pandemia el ejecutivo ha pasado a tener una relevancia especial e importante en toda la ciudadanía pero por primera vez las decisiones que toma el ejecutivo afectan de un día para otro a los ciudadanos esto supone que la gente se fije más en las instituciones y que en ese mirar detenidamente

qué tiene previsto señor lehendakari para garantizar la credibilidad y estabilidad de las instituciones eskerrik asko martínez andrea erantzuteko

legebiltzarburu andrea señora martínez todas y todos los cargos públicos en representación del gobierno vasco estamos comprometidos con un código ético cuya evaluación en su caso corresponde a una comisión de ética pública la ciudadanía confía en las instituciones vascas y concretamente en el gobierno vasco

por su transparencia y por el compromiso de mejora continua permanente y recuerdo las valoraciones máximas en el contexto de las regiones europeas

las críticas de los distintos grupos parlamentarios al gobierno han sido hoy notables me refiero a las que tienen fundamento no a las meramente oportunistas o partidistas

le voy a recordar algunos hitos que en la sociedad vasca están ocasionando un más que evidente

unos ciudadanos a los que se les responsabiliza de manera continuada pero que no entienden las medidas impuestas ya que muy habitualmente contradicen decisiones anteriores le voy a enumerar algunos hechos para ubicarnos primero la situación en el departamento de salud y osakidetza

la falta de un protocolo claro el escaso porcentaje de vacunación

desastres que tienen que ver con los recursos humanos y la organización

dese vox leímos el otro día la entrevista en el correo al señor sabas allí se ponen de manifiesto todas estas cuestiones y se evidencian todos los problemas la ha leído usted qué va a hacer con la máxima responsable de este departamento

el que más desconfianza genera tenemos un segundo punto el nombramiento del coordinador del comité técnico del covid diecinueve

un hombre sin formación científica cómo explicar a la sociedad que un señor sin capacidad de análisis científico tiene que coordinar las medidas y decisiones tomadas

tercero la aceptación por parte del gobierno de que las medidas se hacen

cómo explicar la condena impuesta entonces a la hostelería sin la existencia de certezas concretas de que ahí es donde se producen los contagios qué función tiene entonces ese comité de expertos si todo se fundamenta en los informes de la universidad pennsylvania

y por otro lado otro punto más el bochornoso vídeo de varios políticos de su partido del pnv desde las puertas de la fundación de sabino arana

creo recordar que entre estos políticos se encontraban rementeria ortuzar y creo que también el señor esteban era usted conocedor de estos hechos podría enumerar muchos más acontecimientos pero el tiempo corre en contra y no nos da para más

es esta la idea que maneja el partido nacionalista vasco para garantizar la credibilidad institucional eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez la verdad es que me ha sorprendido

ya me lo podía suponer me lo podía imaginar no lo de la universidad de pennsylvania en todo caso

han adoptado medidas en todo momento han dado cuenta de ellas las han actualizado cuando ha sido necesario para evitar que situaciones así se puedan repetir en el futuro

acreditan esa confianza con su servicio público a la ciudadanía cada día mire rigor significa contar con mecanismos de reacción ante el incumplimiento de un protocolo así se ha hecho y en cuanto fueron detectadas las dos irregularidades graves se activó una respuesta rápida y se exigieron responsabilidades

inmediata y contundente y la reacción ha sido por lo tanto ejemplar y ejemplarizante están ya de sobra referidos los hechos en los hospitales de basurto

usted pregunta por las medidas a adoptar ha sido la propia consejera quien explicó aquí y ha dado a conocer las medidas puestas en marcha se ha actualizado la metodología organizativa interna de la vacunación que se venía utilizando y que se correspondía con la campaña de la gripe ahora se ha centralizado la responsabilidad de la vacunación en la dirección asistencial de osakidetza

y los centros sanitarios se han reforzado los medios y controles para que esto no vuelva a repetirse desearía señora martínez al margen de todas las consideraciones que ha hecho al partido nacionalista vasco etcétera que no voy a entrar en ese juego desearía señora martínez que no se volvieran a repetir este tipo de problemas

en todo caso puedo garantizarle a usted y a toda la ciudadanía que los controles funcionan y que el gobierno vasco está comprometido con la transparencia y la honestidad también puedo garantizarle que osakidetza seguirá funcionando a pleno rendimiento atendiendo a todas las personas a todas

no solamente a las del pnv a todas las personas que necesiten sus servicios y que cumpliremos el calendario de vacunación tal y como está planificado y que

baina azalpenak eman ahala akatsik ez zen onartu silogismo perverso aquel pido perdón por lo que hayamos hecho mal pero no hemos hecho nada mal así que pido perdón por nada

baina sentimenduez gain erantzukizun politikoak dituzu eta hortaz ere hitz egin behar duzu porque en zaldibar a falta de aclarar casi todo hay una evidencia

y veremos si la empresa tiene responsabilidades penales lo que sea pero además

tienen que fallar los sistemas públicos de control bien porque los instrumentos de control no se aplicaron con diligencia porque eran insuficientes en cualquier caso requiere asumir responsabilidades y mejorar el sistema además de provocar sentimientos por nobles que sean y queremos llegar al fondo

y al fondo de la verdad y yo no sé por qué se cayó el vertedero pero lo que sí sé es que nadie tenía ni tiene elementos suficientes para decir como dijo el señor arriola

las causas no están determinadas eso sí hay hilos de los que tirar mucho que aclarar

lakua permitía por silencio administrativo técnicas de mezclado de residuos contrarias en principio a la directiva europea

y que una vez derrumbado lakua sabemos que tuvo errores de bulto

entre otras cuestiones los controles fallaron y la descoordinación tuvo consecuencias y no se depuraron responsabilidades hay que seguir investigando por higiene democrática y no debe haber ni mayorías ni pandemias

más cuando los expreso cuando se me pregunta por mi parecer y por mis sentimientos en todo caso

hasta el día dieciséis de agosto yo creo que es evidente todo lo que hicimos pero además quiero subrayar que desde el día dieciséis de agosto cuando se encontró el cuerpo

se mantiene la búsqueda de joaquín beltrán sin descanso hubo quien puso en duda el año pasado

íbamos a proceder a la búsqueda hasta el cinco de abril y luego nos olvidaríamos

el gobierno vasco ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales todos los hechos y ha trasladado a la fiscalía información actualizada de las actuaciones realizadas

y tal y como comprometimos en sede parlamentaria el gobierno ha solicitado auditorías externas e informes de causalidad y esta documentación en poder de esta cámara y de la fiscalía que primero los requerimientos legales se cumplen y responden a lo establecido en las directivas europeas de vertederos y de emisiones industriales y segundo cumplen asimismo las previsiones de las citadas normativas europeas vamos a mantener el compromiso adquirido ante esta cámara señor otero responsabilidad

garantizando la seguridad del operativo y la salud pública habiendo mantenido informadas a las familias de manera puntual

hemos abierto diligencias para que la verdad prevalezca y los hechos sean juzgados el gobierno va a exigir todas las responsabilidades de modo exhaustivo riguroso y completo

nuestra determinación es mejorar la gestión y tratar de evitar que algo así se vuelva a repetir responsabilidad rigor y transparencia

gracias señora presidenta miembros del gobierno señor lehendakari señorías se presenta una

que el gobierno exprese su parecer para que el gobierno

de las competencias relativas a la organización régimen y funcionamiento de los servicios penitenciarios lo que se suele llamar como el traspaso de prisiones

entiendo que hay al menos hasta tres consejerías o departamentos involucrados

la señora artolazabal porque al final parece ser que le tocará a ella gestionar

garamendi porque efectivamente hay unas cuestiones aquí técnicas que hay que establecer

en el señor erkoreka como vicepresidente que según los decretos de estructura y demás del gobierno parece que es el responsable de llevar un poco el tema de las transferencias

bastante leña le están dando ya en todo caso otro día tendremos oportunidad de debatir no pero en fin le agradezco

la gentileza de anunciarme que el gobierno había establecido que le correspondería a la señora garamendi la respuesta por parte del gobierno a esta interpelación bien

desde hace meses se han intensificado las declaraciones de destacados miembros del gobierno central del gobierno vasco de las que se han hecho eco los medios de comunicación pues relativas a un traspaso final

para completar o para establecer lo que sería la puesta en funcionamiento de los servicios penitenciarios por parte

la pasada legislatura este parlamento celebró un pleno monográfico sobre el modelo penitenciario se titulaba qué necesitamos en álava bizkaia y gipuzkoa en el que se aprobaron una serie de resoluciones sobre esta cuestión también hay un documento por ahí

acceso que lo hizo la dirección de ejecución penal hay una errata por cierto en la interpelación no era penitenciaria dirección de ejecución penal

hablaba también de ciertos aspectos relativos a lo que podía ser el modelo que parecía que el gobierno vasco pretendía establecer distinto

el caso de euskadi pero hay una serie de elementos yo creo que de suficiente complejidad e importancia que esta documentación no ha abordado y estos debates no han abordado

comparecencias sobre estas transferencias siempre se ha criticado en términos generales la negativa de los gobiernos de turno de establecer o de completar ciertas transferencias de medios para llevar a cabo las competencias que ya reconoce el estatuto no hay que recordar la competencia del actual estatuto luego faltan los decretos de transferencia donde se produce una negociación porque al fin y al cabo sí que hay

a mí lo que me preocupa de esto es la forma en la que se lleva a cabo este tipo de negociaciones siempre son oscuras

me preocupa que nunca se piense de qué manera se va a ejercer mejor la competencia sobre todo justificar de qué manera se ejerce mejor de forma más eficiente una determinada competencia por parte de las administraciones ya sea la central la autonómica oiga podía ser la foral la local etcétera

esto consejera me permite la licencia pero siempre se presenta el tema este de los traspasos de competencias como un perdón traspaso de medios y tal como una cuestión de agravios que si está pendiente que si tal siempre quedan treinta competencias eh siempre quedan treinta o sea pueden transferirse diez quince doce pero luego otra vez

que esa es otra cuestión también de interés nos prometió usted un informe jurídico firmado

en fin lo estamos esperando la comisión supongo que lo estarán terminando de elaborar o de revisar y bueno tenemos esta transferencia

bastante de cerca lo he seguido muy de cerca y de repente

alguna cuestión salió en las comparecencias iniciales de la señora consejera

se completará o se establecerá esta transferencia

nos enteramos el treinta de diciembre que parece ser que hay un borrador entre el gobierno central y el gobierno vasco sobre esta cuestión

pero bueno pues el treinta de diciembre se hace a mí que realmente ciertamente me interesa esta cuestión

yo pienso y además que esto es una responsabilidad compartida por parte en este caso de los gobiernos vasco y central de la opacidad y la improvisación de la forma de llevar a cabo una transferencia de esta naturaleza que es delicada en muchos aspectos pero que también es compleja técnicamente entonces bueno yo he intentado recopilar la información necesaria entonces

tipo libro blanco que sería una costumbre bastante buena por parte de su departamento implantar este tipo de costumbres para poder debatir poder luego entre todos que siempre dicen cuando presentamos la oposición alguna iniciativa que nunca

no encontré nada además está sin actualizar desde hace bastante tiempo dije bueno

la transferencia de medios pues habrá también una posible reasignación de recursos en función de los medios no tampoco luego dije bueno voy a mirar la ley de cuerpos y escalas

tampoco he visto unos cuerpos específicos para el tema de prisiones digo bueno pues la consejera informará a la comisión de gobernanza tampoco he visto que no se ha informado sobre esto no he ido a todas digo bueno voy a preguntar a los funcionarios tampoco saben los funcionarios digo hombre los sindicatos

bueno venga sí los sindicatos se han reunido hace muy poquito se han reunido al menos lo que a mí me transmiten es que hay o lo que yo he entendido

en el ámbito central a ver si por ahí hay algo no parece ser por ahí he escuchado que sí que la semana pasada se pusieron en contacto

los niveles comprobar sobre todo niveles y complementos salariales no sé si al hilo de esta interpelación lo tenían pensado pero en todo caso esto está vamos el borrador este que parece que han negociado entre los dos gobiernos

y hombre yo creo que sería muy conveniente que fuese público y sobre todo que lo pudiéramos discutir y sobre todo ver en qué condiciones se va a producir este traspaso de medios yo creo que aquí pasa lo que ha sucedido siempre con las competencias y con los traspasos de medios

el que siempre hemos construido además el estado de las autonomías

consigo por debajo un poco más y tal y al final estos son tantos políticos que se van apuntando

al gobierno central pero son muchísimas las cuestiones que están abiertas y que yo creo que el gobierno vasco

luego en el siguiente turno le daré algunos datos por eso quiero escucharla primero a ver qué nos tiene que contar pero en fin para conocer honestamente cuál es

interpelación por eso me interesa mucho y yo creo que a este parlamento y a la sociedad a los funcionarios a todos

de este gobierno en torno a la forma es decir de qué forma se va a llevar a cabo el traspaso de los medios materiales y humanos a euskadi para el ejercicio

y funcionamiento de los servicios penitenciarios muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

previamente hemos acordado un calendario y unos bloques de materias para ir ejecutando los traspasos una de las materias contempladas en ese calendario como usted indica es la relativa a la gestión de los centros penitenciarios me pregunta concretamente por el propósito del gobierno en torno a la forma en la que se llevará

y para ser conscientes de la dificultad y el calado que entraña todo el proceso negociador creo que resulta pertinente desgranar todos y cada uno de los pasos que conforman este procedimiento como bien sabe la disposición transitoria segunda del estatuto de gernika contiene la previsión básica

dispone asimismo que serán respetados todos los derechos adquiridos de cualquier orden y naturaleza que en el momento de la transferencia tenga el personal

objeto de la misma efectivamente compartimos en primer lugar la apreciación de que hasta la fecha el parlamento vasco desde su pleno monográfico celebrado el trece de marzo de dos mil diecinueve ha examinado únicamente

consejera de igualdad justicia y políticas sociales es la persona competente para abordar los pormenores de lo que será una nueva política pública de la que se haga cargo este gobierno una vez se materialice la transferencia compartimos asimismo

que reviste la transferencia cualquier transferencia antes y muy a pesar de la tardanza y del tiempo transcurrido para poder abordar esta cuestión

en negociación bilateral logremos un acuerdo sobre las funciones y servicios que en materia penitenciaria debe asumir la administración vasca y que debe dejar de ejercer en euskadi la administración del estado todo ello subrayo en aplicación del estatuto de gernika nuestro propósito por tanto estriba en alcanzar

prevista en el estatuto los acuerdos pertinentes entre ambos gobiernos en torno a los medios humanos y materiales que existen para ejercer las competencias de euskadi

por el que se interesa en su interpelación elaborar y aprobar el texto de un acuerdo en el que se expresen al menos los siguientes seis extremos

por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios del estado a la comunidad autónoma de euskadi en primer lugar la competencia de ejecución de la legislación del estado en materia penitenciaria con cita de los preceptos del estatuto que lo recogen

en segundo lugar designación de los servicios e instituciones que se traspasan con su denominación organización y funciones

por tanto en el marco de la legislación establecida por el estado las funciones de dirección supervisión organización gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en nuestro ámbito territorial asimismo se detallarán las funciones que se reserva el estado

en materia penitenciaria así como el establecimiento de criterios de coordinación y la correspondientes fórmulas de cooperación con concreta referencia al real decreto

sobre normas provisionales de coordinación de las administraciones penitenciarias en tercer lugar se recogerá el inventario detallado de los bienes

o que pertenezcan por cualquier título a las instituciones que se traspasan todo ello

de la comunidad autónoma de euskadi en su titularidad el cuarto de los elementos a detallar son las relaciones nominales

a los servicios e instituciones que se traspasan y la relación de puestos de trabajo vacantes con sus respectivos datos asimismo

del ejercicio corriente que van a quedar comprometidos ya que reflejan el coste total anual a nivel estatal asociado a las funciones y servicios a traspasar a efectos de cálculo de la parte del cupo a detraer en sexto y último lugar se fijará la fecha de preceptividad del traspaso

de los expedientes y documentación aneja en cuanto a la valoración de los servicios transferidos para euskadi el concierto económico

las cargas totales que constituyen el presupuesto de gasto del estado y las cargas asumidas por la comunidad autónoma que se detallan en los decretos de transferencia

deberían de indicar la asignación presupuestaria íntegra que a nivel estatal corresponda a los servicios transferidos por su parte la ley once barra dos mil diecisiete

regula los efectos por variación en las competencias asumidas estas técnicas valorativas tienen un exponente clarificador en el acuerdo uno barra noventa y cinco de quince de marzo de modificación del método para el cálculo del coste de servicios transferidos a las comunidades autónomas en dicho acuerdo se recoge un apartado específico de la aplicación de la metodología del sistema del concierto y el convenio económico a estas normas

la ley de proceso autonómico a su vez se detiene en el personal funcionario cuyos servicios sean transferidos y que pasen a depender de las comunidades autónomas así como advierte de la reestructuración de la administración del estado como consecuencia de la transferencia de servicios como puede apreciarse el proceso de traspasos

es totalmente transparente y está perfectamente protocolizado en todo este compendio de normas a las que me he referido cierto es que la lectura fría

a los contactos bilaterales en la negociación y concreción de los contenidos que se expliciten en el acuerdo que alcance la comisión mixta de transferencias para ello las representaciones de ambas administraciones sostenemos reuniones técnicas grupos de trabajo

los bienes personal obligaciones y contratos además de su correspondiente valoración económica global tan importante como materializar la transferencia es hacerlo con total seguridad jurídica y en condiciones óptimas a día de hoy contamos con un borrador donde se perfilan las funciones y servicios a transferir

y las consiguientes ponencias técnicas en el caso de la ejecución de la legislación penitenciaria se ha pergeñado en torno a una serie de encuentros periódicos hasta que se consiga un acuerdo a ser posible antes del treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno a partir de la consecución de dicho acuerdo en el seno de la comisión mixta de transferencias seremos los respectivos gobiernos quienes aprobemos y publiquemos la norma donde se anexe dicho acuerdo en este punto

no me gustaría dejar sin subrayar que si bien es importante contar con un cronograma pactado que nos sirva de guía para trabajar cada uno de los traspasos

por parte del estado es igualmente importante concretar y definir técnicamente todos y cada uno de los detalles

que no lo tienen claro me queda claro que no saben por dónde les va a dar el aire en esta cuestión que insisto es delicada ustedes lo han vendido siempre como un tema político y demás

pero esto es una competencia y es una labor de la administración insisto delicada compleja y el manual de instrucciones lo conocemos pero

que según lo que me ha contestado usted no parece que hayan tenido en cuenta vamos a ver está el tema de los medios digamos inmobiliarios los edificios que además en la nota de prensa que sacaron

por los edificios y demás de acuerdo yo no sé qué se espera encontrar usted en las prisiones

va a costar un dinero no veo una previsión hay unas licitaciones por ahí de más imagino que se subrogarán en fin de acuerdo pero

de los internos en euskadi hay unos mil trescientos internos

pues están permanentemente menos de la mitad de esta cifra unos seiscientos yo no sé si usted está al tanto de que los primeros que son pocos y los segundos grados de personas que les correspondería estar en prisiones

se envían a prisiones de fuera de aquí sobre todo segundos grados es verdad que hay setenta y ocho que son miembros de la banda eta y demás

en términos generales segundos grados que todavía están en la prisión

su día completo y están en otras prisiones de alrededor

de que el día después de que se asuma esta competencia la población reclusa en euskadi va a pasar

de mil trescientos a casi cuatro mil eh ese va a ser el efecto de la asunción de competencias

los funcionarios adscritos más personal laboral en estos momentos un poquito más de

las últimas rpt ahí anda la cosa unos setecientos funcionarios no es mucho más

también hay que ver insisto yo creo que se ha perdido una oportunidad importante en la ley de cuerpos y escalas de clarificar la situación de los funcionarios a los que han mantenido en todo este proceso

en una situación de bastante opacidad algún problemilla dice no es que se reconocerán los derechos y tal los derechos adquiridos pero hombre algún problemilla están teniendo con los funcionarios traspasados de justicia no que hay algún pleito por ahí

no vamos a tener bastantes funcionarios las prisiones están

y un gran número de presos se transfiere a otras prisiones porque es que el sistema que hay

para dar salida a esta situación por eso el sistema global al final permite

esta situación yo le voy decir lo que va a pasar lo le voy a decir lo que en mi opinión va a pasar aquí

están improvisando porque yo creo que no han hecho un análisis de los medios va a aumentar la población reclusa efectiva en euskadi pero se va a triplicar eso es lo que va a suceder los funcionarios además van a tener una sobrecarga importante de trabajo y luego ya lo último

privatizarlo al tercer sector quieren dejar a los funcionarios simplemente para que gestione el papeleo y demás y que luego sea el tercer sector posiblemente de asociaciones y demás que sean afines a ciertos grupos a lo mejor de presos

la función de la reinserción social por eso me deja muy preocupado y espero que en el turno de réplica me puede avanzar alguna información adicional muchas gracias eskerrik asko

usted me interpelaba por la forma de hacer que tenemos prevista y eso es lo que he pretendido trasladarle siento no haber satisfecho su interés

he dedicado toda mi intervención a desgranar con detenimiento el marco normativo que regula la manera de proceder a la hora de abordar el traspaso de una competencia

deben expresarse en el texto del acuerdo que pudiera elaborarse y firmarse una vez alcanzado el acuerdo entre las partes competencia designación de servicios inventariado relaciones nominales créditos presupuestarios fechas de traspaso laburbilduz

de que usted ha planteado esta interpelación no para conocer cómo tenemos previsto trabajar

o el de su grupo parlamentario respecto a la materialización de la transferencia no voy a negarle que como consejera me preocupa estamos hablando de cumplir lo acordado y aprobado en el referéndum hace más de por referéndum hace más de cuarenta y uno años de cumplir el estatuto me preocupa

de ese cumplimiento íntegro como usted ha indicado esta cámara se pronunció sobre las características que a su entender debería de tener un posible modelo penitenciario vasco

parece que usted quiere hablar del fondo aunque en la formulación de su pregunta se haya referido a la forma

esta cámara también se pronunció en numerosas ocasiones sobre el cumplimiento de nuestro estatuto en todas y cada una de ellas el grupo popular vasco

no solo se quedó al margen sino que es emitió su voto en contra ahora mismo

estamos en fase de negociación creo que he sido suficientemente exhaustiva

este gobierno ha conseguido por primera vez un compromiso por parte del ejecutivo español en torno a la necesidad de cumplimentar nuestro estatuto compromiso plasmado en un cronograma de trabajo que por motivo de la situación excepcional de pandemia

así que tratándose de un tema de tanta enjundia y significado político y jurídico no es extraño que ahora que tenemos un calendario de transferencia pactado intensifiquemos el diálogo para cerrar un capítulo que siempre ha avanzado por el empeño vasco frente a un estado en demasiadas ocasiones reticente el compromiso político es claro

estamos cerca de dar otro importante paso adelante en todo este camino de más de cuarenta años nada más

andrea el pasado veintiuno de enero tenía lugar una protesta

realizada por diversos colectivos para la defensa de derechos sociales y junto a ellos algunas organizaciones feministas para denunciar un recorte en el acceso

recorte según denuncian para las familias formadas por una persona o para familias formadas por una persona adulta y niños niñas

de veinticuatro meses un recorte que afecta fundamentalmente

y también a personas dependientes este recorte lo origina básicamente instrucción del servicio vasco de empleo que entró en vigor el pasado catorce de diciembre de dos mil veinte estaban ya ustedes los socialistas vascos al mando

que supone un nuevo criterio de lanbide que es perjudicial para las mujeres y para la infancia y especialmente perjudicial para las más vulnerables familias monomarentales y también como decía personas dependientes

un ejemplo real de lo que supone seguramente el más común de los que se están dando y se van a seguir dando si ustedes no toman medidas y revierten esta situación una mujer con un niño pequeño de dos años y un día o una niña de dos años y un día que debido a la

o por cualquier otra razón no puede sostener sus necesidades básicas y se ve forzada a regresar a vivir

ya no puede recibir la renta de garantía de ingresos por lo que pierde esta prestación y su autonomía financiera y pasa a ser dependiente de sus familiares

en familias vulnerables si hasta ahora esto no pasaba y tenían derecho a la prestación durante un tiempo es verdad que durante un tiempo limitado

por qué ahora han perdido este derecho la aplicación de la interpretación que hacen ustedes del decreto correspondiente para la renta de garantía de ingresos

mujeres menores y personas dependientes es duro que pase esto precisamente en esta época pandémica

en la que la realidad nos avisa de familias que están viéndose obligadas a volver a casa de los abuelos de las abuelas o incluso a compartir piso porque no es posible hacer frente a los alquileres abusivos a las subidas en la factura de la luz etcétera

de empleo o incluso familias que ante lo ha acontecido en residencias pues están haciéndose cargo de sus familiares dependientes no se entiende este cambio de interpretación sino es desde una lógica de estrechar el alcance del derecho a la ciudadanía de la renta de garantía de ingresos nosotros les pedimos que no estrechen derechos

por la que estas personas podían cobrar la prestación nosotros nos preguntamos y le preguntamos a usted por qué ahora no estamos ante un caso en el que mediante una instrucción

al documento de criterios correspondiente pues parece que se está dejando sin un derecho a personas

en el propio decreto y una cuestión que para nosotros también es

de lanbide así como de todo el ejecutivo vasco de tener en cuenta el principio del interés superior del menor a la hora de emitir cualquier

limitar el acceso a la renta de garantía de ingresos de niños y niñas porque se les niega a sus madres y padres el derecho

es contribuir a una violencia institucional contra la infancia ahondando en una de sus expresiones más injustas como es la pobreza infantil es un paso atrás

incluso que inmoral en la pasada legislatura se alcanzó un acuerdo en este parlamento

sobre la incorporación del interés superior de niñas y niños y adolescentes en todas las políticas públicas y actuaciones de la administración pública

se instaba al desarrollo de un plan que permitiera dicha incorporación en base a las recomendaciones que al respecto ha elaborado el ararteko en numerosas ocasiones en concreto

denegación y extinción de la renta de garantía de ingresos el ararteko emitió la recomendación general dos barra dos mil quince

incluía principios y pautas concretas de actuación para que la protección y defensa de los derechos de la infancia

y apoyo a las familias instando a mantener un equilibrio adecuado entre las políticas universales destinadas a promover el bienestar de toda la infancia y los enfoques específicos encaminados a apoyar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y pensamos que desde luego este es el caso señora mendia la interpelación que hemos registrado que usted conoce y que dice textualmente si puede explicarnos usted cómo ha sido ponderado

en la instrucción aprobada y que está resultando en la negación por parte de lanbide de la renta de garantía de ingresos para unidades convivenciales especiales

en vista del resultado que estamos viendo y que están denunciando diversos colectivos pero

pero sobre todo queremos aprovechar para decirles que pongan solución a esto porque esto perjudica

como he dicho familias monomarentales mujeres menores y personas

en situaciones muy complicadas para tirar adelante en su día a día

que no puede ser marca de la casa este tipo de recortes en derechos y prestaciones por parte de lanbide señora mendia por eso le pedimos le preguntamos

pero sobre todo le pedimos que hagan lo que tengan que hacer para revertir
esa situación que perjudica a tanta gente eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko

estos presupuestos lo van a hacer con cuatrocientos cincuenta y nueve coma cinco millónes de euros

con más cuantía en cada hogar que lo necesita y ojalá la semana que viene esa decisión que es firme y que ya está garantizada cuente con un respaldo mayor como primer apunte este señor hernández se nos acusa de recortar a los únicos que vamos a hacer posible ese aumento en la inversión social

lo que nos trae hoy no ha sido su preocupación en ninguna conversación que hayamos tenido en días precedentes a esta interpelación en ninguna solicitud

porque si hubiera habido una solicitud de información documentada hubiera sabido que esto no es solo una instrucción que nace del aire sino que hay una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco por detrás en ninguna aportación que haya realizado en la negociación presupuestaria con este gobierno de donde nos cabe deducir que lo que se presenta hoy de forma tan sangrante para ustedes no lo era hace tres días usted me pregunta si ponderamos el interés superior del menor

usted duda de que la ley proteja a familias monoparentales y yo le digo que no dude la actual ley protege al menor y el decreto que lo desarrolla también y atiende a las familias monoparentales y me voy a ir a los datos

a cierre del año veinte el treinta por ciento hasta dieciséis mil quinientos ochenta y siete son unidades de convivencia con menores y de ellas

el noventa y tres por ciento y no no es un buen dato desde el punto de vista del riesgo de exclusión porque demuestra una vez más la vulnerabilidad de las mujeres pero sí es un buen dato desde el punto de vista de la protección porque vemos que el sistema que tenemos responde así que quienes hemos venido construyendo y quienes nos sentimos progresistas antes de hacer cualquier análisis reconocemos primero la virtud del modelo y el compromiso por mejorarlo pero lo vamos a hacer desde esa convicción que es una de las mejores inversiones que hemos hecho como sociedad y lo digo absolutamente con convicción política e institucional y lo digo apoyada además en la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales de euskadi que es del año dieciocho y le leo lo que dice el sistema de garantía de ingresos que configura la rgi la pcv

de forma dominante en los colectivos con problemas de acceso al bienestar el cincuenta coma nueve de las prestaciones y ayudas se dirigen a colectivos afectados por la pobreza real en la actualidad con otro treinta y cinco coma nueve en situación de ausencia de bienestar

esto supone una concentración del noventa y ocho coma siete por ciento del gasto realizado en los colectivos con mayores dificultades sociales así que el interés superior del menor está protegido por la renta de garantía de ingresos y no está suficientemente protegido por la actual ley

la pasada legislatura y ustedes los grupos parlamentarios de esta cámara no nos dieron chance por eso la vamos a cambiar en esta y espero que esta vez sí quieran permitir el cambio esa es la respuesta directa a la pregunta que plantea más allá de que en la justificación

que no es cierto pero usted tendrá que saber por qué le reitero hoy que nuestra determinación es conseguir una ley

llegue a quien ahora no llega pero está en condiciones objetivas de necesitarlo llegue con más intensidad a los hogares donde hay menores y personas mayores

de generar condiciones de empleo dignas con salarios dignos pero este departamento no se va a refugiar en cifras

por eso y como sabrán está ya en marcha el proceso administrativo para reformar y mejorar el sistema de protección en los términos en los que me comprometí desde el minuto uno de esta legislatura

y la presentación de un texto que este parlamento podrá debatir y al que su grupo junto con el resto de la cámara podrán aportar ese texto tomará como referencia la proposición de la pasada legislatura las comparecencias que se siguieron en esta cámara la integración del ingreso mínimo vital

con representantes del tercer sector ese es el estado de la cuestión señor hernández mientras tanto le diré lo que hacemos lo que estamos haciendo es cumplir la ley vigente y cumplir una sentencia firme que dice que el criterio a aplicar en el caso de familias monoparentales con hijos mayores de veinticuatro meses es el que se viene aplicando hay otras sentencias evidentemente pero la del tribunal superior de justicia

y es la que se recuerda en la instrucción de diciembre porque ese tribunal señor hernández se lo digo para su conocimiento es la última instancia competente

derecho autonómico así que si lo que le pide al gobierno vasco es que prevarique la respuesta que le tengo que dar es no si usted me dice que atienda a las nuevas convivenciales le diré que lo haremos las que usted cita y otras que puedan tener consideración especial de unidad de convivencia porque es verdad

a las personas que viven solas que son la mayoría de quienes reciben estas prestaciones y cubre de forma más débil a las unidades convivenciales con hijos

o no por eso decidimos en la pasada legislatura cambiar la ley así que lo que dice la sentencia y por tanto la instrucción se refiere a las excepciones que prevé la ley y el decreto que lo desarrolla en lo que tiene que ver con las unidades convivenciales

en un mismo domicilio puede haber dos unidades convivenciales beneficiarias entre otras causas para proteger una nueva realidad que es el nacimiento de un niño o niña

y establece el tiempo de protección especial en dos años una medida excepcional ante un acontecimiento excepcional que da lugar a una nueva unidad familiar y es el que se aplica y es el que protege a esas familias que ya he citado antes lo que no excluye que por otras razones pueda haber unidades convivenciales especiales

doscientos noventa y uno unidades familiares con esas características y con eso por delante

mi departamento está en las soluciones a los problemas y trabaja ya en un modelo consolidado que además tiene que integrar a un modelo que está en construcción que es el ingreso mínimo un modelo que quiere llegar mejor a los pensionistas a los hogares con menores y que quiere fijarse no solo en el derecho a una renta sino en el derecho a la inclusión social y laboral

nosotros le seguiremos pidiendo explicaciones sobre las cuestiones que nos parezcan oportunas utilizando los plenos de control y sinceramente a mí

que a nosotros nos preocupan algunas cuestiones en base a las solicitudes de información previas que le hayamos hecho mire yo he tenido conocimiento de este asunto el pasado fin de semana cuando decidimos interpelar sobre esta situación es una situación

más vulnerable y creo que en eso estaremos de acuerdo y por lo tanto me parece una obligación fundamental de un grupo de la oposición

rápidamente a usted sabiendo que hay un pleno de control inmediatamente esa semana nosotros no hemos venido a discutir en términos políticos sobre la renta de garantía de ingresos y me parece también igualmente decepcionante que usted a una cuestión muy concreta sobre la que nosotros le hemos interpelado

lo abra y además de una manera acusatoria

a que si el interés superior del menor no está incorporado en las leyes de renta de garantía de ingresos pues tiene que ver con que en el anterior legislatura nosotros no lo hayamos dado chance

se trata de que no hubo un acuerdo digo yo que la misma responsabilidad tendremos nosotros que ustedes

usted dice que no hay recortes nosotros le hemos venido a hablar de un recorte concreto

yo he escuchado su explicación sobre una sentencia que les obliga a ello pero el recorte existe y nosotros lo que le pedimos es que actúen

que prevarique yo podía desconocer la sentencia

previamente ustedes ya sabían que esta cuestión pues se podía estar dirimiendo y ya llevan ustedes

desde septiembre y esto pues sabían que iba a poder tener este resultado

también se podían haber anticipado yo no le voy a pedir ahora ni le voy a exigir responsabilidades de que no se hayan anticipado a esta situación nosotros lo que venimos a decirles

lo más pronto posible esta situación porque van a perder el derecho a la renta de garantía de ingresos en el corto plazo antes de que se hagan las reformas que usted nos anuncia

que lo necesitan familias especialmente monomarentales

y con personas dependientes a su cargo por una cuestión de interpretación que muy bien ahora hay una sentencia detrás

injusta y que hasta hace un mes y medio se interpretaba dos años y ahora se interpreta pues que dos años de edad y por una cosa que parece

pues se va a quedar sin esta prestación mucha gente que lo necesita realmente por eso nosotros no hemos venido aquí

que además ustedes cada vez que les preguntamos sobre una cuestión relacionada con esto ustedes básicamente y usted hoy lo ha hecho señora mendia ha puesto prácticamente en nuestra posición la crítica frontal al sistema de garantía de ingresos que nosotros nunca

y siempre ha valorado un sistema de renta de garantía de ingresos que tenemos

y en la anterior legislatura ustedes propusieron una concreta y nosotros no la compartíamos y dijimos por qué nosotros ni les dimos chance ni les dejamos de dar chance teníamos visiones diferentes

que en esta legislatura aunque tengan ustedes mayoría absoluta podamos coincidir porque nos parece un tema muy importante nosotros no venimos ni a destruir sus posiciones sobre la renta de garantía de ingresos ni a hacer politiqueo con ellas no es responsabilidad

son posiciones diferentes que esperemos que esta vez encuentren un punto en común pero hay cuestiones concretas que mientras hay que intentar resolver

este parlamento debate es política porque a través de la política hacemos políticas públicas que redundan en beneficio de la ciudadanía y en todos los campos de la vida y de la economía por lo tanto es bueno que hablemos desde una visión política porque es la política la que nos ha traído a esta cámara y de verdad señor hernández usted dice que hace tres días tuvo conocimiento pero yo que sigo un poco la actividad de esta cámara sé que hay otro grupo que hizo previamente una

que hay una sentencia y hay una proposición no de ley interpuesta en esta cámara sobre esta misma cuestión pero en cualquier caso

una sentencia del tribunal superior de justicia que sienta jurisprudencia

cualquier capacidad de recurso a otra instancia superior con respecto a la legislación autonómica por lo tanto al gobierno vasco no le cabe más que cumplir y nosotros no hemos cambiado de criterio el criterio estaba establecido y nosotros no hemos hecho recortes

mejor es llevar la ley de la renta de garantía de ingresos a su reforma cumpliendo los plazos comprometidos en esta cámara y por lo tanto que llegará

para poder aprobarla cuanto antes insertar en ella el sistema todavía pendiente de cierre completo del ingreso mínimo vital

con un objetivo que compartíamos en la legislatura pasada y que era llegar a gente que lo necesitaba y que con la regulación vigente vemos que no llega en concreto las personas mayores y en concreto las unidades de convivencia

por lo tanto ese es el objetivo principal de la reforma que arrastramos de la legislatura pasada y que lamentablemente suceden estas cosas porque en la legislatura pasada no fuimos capaces

esta cámara fue incapaz de alcanzar grandes acuerdos en una legislatura precisamente en las que los grupos de la oposición

en las políticas del gobierno y sin embargo fue una legislatura escasa

en esta ocasión el gobierno es verdad que tiene mayoría y es verdad que tenemos la mano tendida a los grupos de la cámara con voluntad de acuerdo pero es una voluntad de acuerdo que tiene que ir

y yo confío en que podamos alcanzar acuerdos por lo tanto nosotros

simplificar la normativa además de alcanzar esos objetivos de mayor cobertura queremos simplificar la normativa para que sea más sencillo el procedimiento

que solicita la renta de garantía de ingresos pero también para los trabajadores de lanbide que gestionan las prestaciones que da lanbide y queremos como le decía mejorar

atendiendo a especificidades que hemos ido viendo que existen y que quedan fuera de la regulación y queremos hacer una buena gestión de ambas prestaciones que en euskadi van a recibir los vascos la del imv y la de la renta de garantía de ingresos yo desde luego

no solo porque es nuestra obligación sino porque sabe que yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con los grupos de la oposición y darles con absoluta transparencia toda la información sobre cuáles son las actuaciones que está desarrollando mi departamento simplemente me ha sorprendido la falta de

esa sentencia y por lo tanto no nos queda otra que cumplir al tiempo que como le digo el compromiso del departamento en acelerar al máximo la tramitación de la reforma de la ley de garantía de ingresos y de la inclusión social

y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

una vez más vuelvo a traer a esta cámara el tema del aeropuerto de hondarribia es un tema que

por ejemplo desde el año mil novecientos noventa y tres solamente

iniciativas respecto a este tema pero es que

es lehendakari se han registrado en esta cámara veintidós iniciativas referidas a este aeropuerto y sin embargo lo vuelvo a traer porque el problema sigue estando ahí está sin solucionar y sigue siendo un problema grave al menos para gipuzkoa

porque el aeropuerto está languideciendo poco a poco y ya está en una situación bastante deplorable

la pista del aeropuerto que es la verdadera y definitiva solución por ello señor consejero

qué actuaciones está llevando a cabo el gobierno o tiene pensado realizar a corto plazo dirigidas al desarrollo y potenciación del aeropuerto de hondarribia y en qué situación se encuentran a fecha de hoy gracias

bien conoce este gobierno no gestiona el aeropuerto de hondarribia no obstante está presente en el mismo a través de su participación en la sociedad ortzibia

dentro del marco competencial que le corresponde y lo hace junto a la diputación de gipuzkoa a la cámara de comercio y los ayuntamientos de donostia san sebastián

el contexto de pandemia que estamos viviendo está teniendo un efecto muy severo en muchos sectores de la economía

se está centrando en estos momentos principalmente en limitar el impacto de las posibles reducciones de vuelos por parte de las compañías que operan en hondarribia y en paralelo

está trabajando para que en cuanto las condiciones lo permitan el aeropuerto de hondarribia recupere

ampliar rutas y servicios eskerrik asko arriola jauna gil jauna zurea da hitza señor consejero

pensamos que es un tema que tiene mucha tela que cortar una sociedad

pero que sí que tiene presupuesto en todo caso vamos a centrarnos si le parece

hace veintiocho años un parlamentario hizo en este salón exactamente la misma pregunta que acabo de hacer yo y me he dado cuenta después de haberla hecho ese parlamentario se llamaba gregorio ordóñez y la semana pasada

y su memoria y su recuerdo siguen inspirándonos a muchos de nosotros por su valentía y su integridad el segundo

es que el treinta de enero del año dos mil trece otro parlamentario bien conocido por el señor consejero volvió a insistir en el tema con una pregunta parecida dirigida a la entonces consejera de medio ambiente y política territorial este parlamentario era del partido socialista y se llamaba iñaki arriola

cuando fue nombrado consejero de planificación territorial todos estábamos

que tanto le preocupaba hace ocho años pero el problema lo seguimos teniendo ahí es por tanto un tema recurrente y un tema pendiente

y creo que ya va siendo hora señor consejero de que una vez por todas este gobierno tome el toro por los cuernos y resuelva este asunto gestionando

y que paradójicamente fue paralizada con el acuerdo del psoe que lleve jugando a dos bandos con este tema demasiado tiempo gracias

yo realmente no sé de dónde saca usted que

está abandonado y que este gobierno no lo tiene en cuenta porque al margen de lo que es la situación especial del año dos mil veinte las cifras

record de pasajeros en el aeropuerto de hondarribia un record que estaba en el año dos mil nueve en otros tiempos en que me tocó a mí tener la responsabilidad de transportes y que se ha batido se batió en el año

en la coyuntura actual estamos en una situación especialmente complicada derivada de la crisis del covid y en este sentido la situación del conjunto de lo que es el transporte aéreo en españa es que se ha producido una reducción de pasajeros entre setenta y el ochenta por ciento y hondarribia no es ajeno a esto

de aeropuertos que tenemos en españa lo cierto es que con las limitaciones que tiene este aeropuerto

que funciona en los últimos años

y es lo que tiene previsto este gobierno seguir apoyando esta gestión de promoción del aeropuerto para que en los próximos años la dinámica que se había conseguido en los años pasados se pudiera

que se siga trabajando como se está trabajando con relación a las compañías aéreas para abrir nuevas rutas nuevos servicios y eso es en lo que estamos trabajando

no tenga usted ninguna duda que nos preocupa hondarribia como nos preocupa el aeropuerto de bilbao y el aeropuerto de vitoria

limitadas en estos momentos porque la competencia de gestión de los aeropuertos todavía no las tenemos en nuestras manos seguiremos trabajando para desarrollar esa

como se ha venido haciendo en los últimos años y trataremos de superar los obstáculos posibles para que esto sea así decirle

que la coyuntura por la que está pasando es especialmente complicada como el resto de aeropuertos y en este sentido teniendo en cuenta la situación nosotros hacíamos una aportación a la sociedad ortzibia

y vamos a seguir trabajando como le decía para que en la medida en que la situación se vaya normalizando

esta autorización ambiental integrada ha realizado ocho visitas de inspección a la instalación

de la autorización ambiental es decir desde el dos mil siete hasta el dos mil once que se inicia se realiza la primera visita

que dan respuesta a todas las exigencias en materia de inspección dos visitas

y gestión de residuos todos ellos bajo el plan de inspección y control previsto

el último desde luego en el periodo dos mil diecinueve dos mil veintiséis todos estos planes y programas de inspección responden a lo que se denomina el procedimiento

seguimos todas esas eh esos procedimientos

todas estas visitas tienen sus correspondientes actas y desde luego realizamos todas las inspecciones programadas requeridas de acuerdo con la autorización que tienen pero también se realiza un control adicional de acuerdo con la actividad que se realiza y

una serie de multas en marcha en el dos mil doce y en el dos mil veinte de acuerdo con una inspección realizada en el año dos mil diecinueve eskerrik asko

sin responder que tienen que ver con la actuación del gobierno en concreto por qué no pararon la actividad cuando se avisó de las grietas en el vertedero o cuando el propio departamento ya estaba tramitando un expediente sancionador o por qué no hubo ninguna responsabilidad

de amianto que existían en el vertedero o cómo es posible que un vertedero proyectado para ser cromatado en treinta y cinco años resulte que esté lleno ya en simplemente nueve años

en europa la directiva de residuos lleva décadas exigiendo

oportunidad la última opción o por ejemplo en los incendios que se produjeron el siete de febrero se informó el gobierno informó adecuadamente a la población

cuando dijeron que no había alarma cuando poco después se tuvo que

por peligrosidad por precaución y es que en este no asumir y esconder también llama la atención pues la manera en que se produjo la detención de los tres directivos

de dos mil veinte el departamento de seguridad dijo que las detenciones fueron por orden judicial pero luego tanto la empresa como la propia jueza de durango que instruyó el caso que instruye el caso

del país vasco lo desmintieron entonces parece ser que no hubo orden judicial sino que fue una orden policial del departamento de seguridad

claro otra pregunta que surge por qué el gobierno vasco no esperó a la orden judicial entonces es que cabe la duda o cabe la sospecha de que se utilizó a la ertzaintza

del gobierno lo digo además sobre todo porque estas últimas semanas también estamos viendo que el foco mediático

se está eclipsando y desviando hacia

en disturbios y reivindicaciones de trabajadores así que hay muchas dudas

en torno a la catástrofe de zaldibar y en definitiva un año después del derrumbe del vertedero hay como digo hay cuestiones pendientes de resolver y aunque hay muchos indicios de mala gestión y de que en el control del vertedero y de las decisiones tomadas

responsabilidades no hay que olvidar y no tenemos que olvidar que en este mismo parlamento se negó la constitución de una comisión de investigación precisamente para averiguar qué es lo que pasó y poder depurar todas esas responsabilidades de carácter político

esta situación de opacidad y de no investigación sea revierta

opacidad no lo ha dicho el lehendakari rigor y transparencia el cuatro de marzo del dos mil veinte se inicia

tras la respuesta recibida se ha determinado el carácter significativo de al medio ambiente realizados por esta empresa lo decía la semana pasada sobre agua subterránea sobre aguas superficiales y sobre el suelo por tanto se ha requerido a la empresa

asimismo se ha requerido auditorías externas como ustedes bien conocen porque se ha remitido a la cámara en cuanto

a lo que es una opinión experta sobre la autorización ambiental integrada

y en el mismo informe se concluye que la autorización ha realizado

y que además en relación a las labores de inspección y control el gobierno vasco dice cumple asimismo las previsiones de las citadas normativas europeas

a una auditoría externa es lo que dice en cuanto a la autorización ambiental y el seguimiento que se ha hecho en cuanto a la inspección y control no obstante no es ese el único informe que se ha solicitado a diferentes entes externos sino que además

mixto una parte a la universidad de barcelona y otro a la universidad de cantabria que ha sido recientemente recibido y ambos documentos por supuesto se encuentran ya en manos de la fiscalía porque

es esclarecer lo ocurrido y trabajar junto con la fiscalía para depurar todo tipo de responsabilidades y si hace falta más información

también lo haremos no le quepa a usted la menor duda eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa mikel

del estado de la situación de los fondos europeos concretamente del mecanismo de recuperación transformación y resiliencia y del enfoque

profundo metodológico estratégico e interinstitucional que ha conseguido plasmar una visión de futuro compartida y consensuada hoy al menos ha reconocido y es de agradecer

el mes de agosto una visión de futuro con un enfoque coherente con nuestras líneas

un programa que plantea un modelo de gobernanza que queda reforzado desde la unión europea con la mirada puesta en construir en aportar y en avanzar

que la gestión por parte del gobierno de españa no está siendo la que nosotros entendemos que es la más eficiente para una óptima utilización de los recursos europeos y para llevar a cabo un proceso de transformación real

del congreso de los diputados un nuevo varapalo en cuanto a la credibilidad de la gobernanza propuesta por el gobierno de españa la anterior

aprobación in extremis del decreto ley que regula la ejecución de los fondos una aprobación que creo debe entenderse como una oportunidad para cambiar el rumbo seguido hasta la fecha y situar la estrategia y la planificación de la recuperación

de las autonomías además durante los encuentros anuales entre la comisión europea y el gobierno de españa

europa insistió en la necesidad de garantizar la esencial complementariedad de los fondos

sin embargo el estado insiste en diferenciar ambos instrumentos resaltando sus diferencias de gestión y omitiendo

y los procesos han sustituido a los propósitos el gobierno vasco pone el foco en defensa de la capacidad de decisión

a las comunidades autónomas nos jugamos demasiado por ponerle varios ejemplos que consideramos preocupantes

se destinan tan solo doscientos cuatro cero coma ocho por ciento a la universidad

se destinan doscientos treinta y tres millónes y todo ello controlado desde madrid más fácil industria cuenta en dos mil veintiuno con el cero coma cinco por ciento del mrr por su parte comercio y turismo que son dos sectores menos intensivos en inversión

protagonismo en la transformación energético ecológica y la digitalización en euskadi

esto es el setenta y cinco coma cinco por ciento del presupuesto del ministerio correspondiente

pensar que estamos a tiempo de aunar esfuerzos y reconducir entre todas y todos estos planteamientos desde el gobierno vasco estamos trabajando en ello con intensidad y lealtad la visión vasca para un plan de recuperación en la unión europea definida en mayo del año dos mil veinte y enviada por lehendakari urkullu a la presidenta de la comisión europea

señalaba cómo el lanzamiento del plan de recuperación exigía una apuesta ambiciosa a la vez que abogaba por su alineamiento

y también con los fondos de política de cohesión en particular con el propósito de lograr un alto grado de coordinación y de coherencia entre ambos instrumentos

la gravedad del momento exigía una respuesta ambiciosa por parte de la unión europea al enfrentarse al reto más importante desde su fundación esta respuesta llegó dos meses más tarde a través de la iniciativa next generation

para rescatar a europa de una crisis económica inédita en tiempos de paz en nuestras manos está que en esta ocasión que no vuelva a suceder un bienvenido mister marshall que es lo que ocurriría si no aprovechamos

no solo para recuperar nuestra economía sino sobre todo para transformarla y hacerla

va mucho más allá de ser un mero listado de proyectos

y contando con las aportaciones de agentes económicos y sociales

ciento ochenta y ocho inversiones contempladas aspiran a captar fondos europeos

lo que unido a los presupuestos propios de las administraciones vascas y a la inversión privada activaría un total

en euskadi durante los próximos cinco años una inversión gigantesca

durante el periodo un gran reto se mire por donde se mire el gran desafío de este programa es seguir construyendo una euskadi verde

se trata de apoyar proyectos que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social la sostenibilidad

las medidas de euskadi next orientadas a la transición energético ecológica alcanzan el sesenta y tres por ciento

europa y las orientadas a la transición digital alcanzan el veintiuno por ciento un punto también superior a lo establecido por la unión europea

nuestras pymes y nuestros municipios podrán acceder a los recursos procedentes

por distintas vías con un enfoque claro de capilaridad decía que su interpelación me recuerda a su propuesta sobre esta cuestión en la negociación presupuestaria

no pretendan asumir un papel que no les corresponde no vamos a confundir los planos

el proyecto presupuestario incorpora un modelo gestor de suficiente

para que el aprovechamiento y maximización de los fondos tenga un seguimiento y control parlamentario riguroso

de su planificación así como la gestión relacional y económica con el estado el gobierno ejerce funciones de gobierno en todos los niveles en la gestión en la representación

el gobierno marca la hoja de ruta en las políticas públicas porque cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca la inteligencia colectiva señor otero se activó el doce de julio del dos mil veinte el gobierno da cuenta a esta cámara como no puede ser de otra manera y los grupos parlamentarios pueden aportar y controlar por supuesto

y para terminar tengo que decirle que esta cámara y su grupo en concreto como promotor máximo de la iniciativa ya tuvo ocasión de participar

por el que usted interpela hoy y lo cierto es que el gobierno no ha hecho más que seguir las resoluciones aprobadas en aquel pleno del dieciséis de diciembre y realizar un trabajo que

el legitimado evidentemente luego también las aportaciones que usted pueda hacer desde luego desde su grupo parlamentario serán bienvenidas pero al gobierno

esaten duzu que estamos a tiempo de aunar esfuerzos pero usted no nos dice cómo

no hay ninguna manera desde el principio del proceso hasta hoy y aún hoy sigue sin habilitar usted ningún mecanismo

otero jauna usted mismo realizó una serie de propuestas en el pleno del parlamento que fueron debatidas y votadas no y yo creo que ese es el camino

el gobierno aquellas propuestas que salen en positivo tienen que retomarlas y utilizarlas para avanzar

apoyo el real decreto ley para tratar un poco de conseguir digamos

el partido nacionalista vasco lo viene haciendo hace muchísimo tiempo y creemos que siempre y cuando esos recursos se destinen

eso es positivo o sea que me parece muy bien que sigan por ese camino

poniendo sobre la mesa distintas iniciativas sobre esta cuestión yo no sé si se refiere al documento de veintiséis páginas entregado al lehendakari en el que únicamente veintinueve líneas eran las que hacían referencia a europa y no había ningún proyecto ni concreto no había ni una calendarización ni estaban cuantificados

de seis páginas que nos presentaron a nosotros hace un mes en la que ustedes pretendían una defensa conjunta en madrid y dar una respuesta conjunta en bruselas o no sé

a lo que públicamente presentaron el domingo veinte de diciembre que el gobierno ese documento no recibió nunca aun así lo analizamos y

cómo ustedes plantean tres áreas que son las marcadas por europa y veintiocho líneas conceptuales pues bien de las veintiocho ideas que ustedes plantean únicamente tres

esas tres son ámbitos que el gobierno trabaja y para los que destina un presupuesto ordinario tema de digitalización impulso al euskera y a la atención a las empresas de esas veintiocho ideas ninguna está cuantificada ninguna está calendarizada y como le decía y ninguna cuenta con el impacto medido en definitiva permítame que me recurra a la

de este proceso diciéndole que esto parece una manifestación de interés poco sólida

y a esta cámara y además les pediría señor otero que no traten tampoco de confundir ni generar tensiones innecesarias que en algunos casos

en algunos ayuntamientos yo creo que hay que darle tranquilidad y expectativas claras a la ciudadanía euskadi cuenta con un plan propio y estratégico para responder con al desafío que nos espera en los próximos años y que afrontamos con ilusión

no vamos a contar con el veinte por ciento de los recursos del estado yo no sé si

que del veinte yo le diría que en los próximos meses sinceramente nos jugamos mucho

la visión de futuro que es euskadi next no podemos permitirnos el lujo de tropezar así que señor otero apoyar y aportar por supuesto pero no poner zancadillas ni obstaculizar

trabarik eta zailtasunik jarri gabe euskadi no puede perder no puede perder ni un minuto porque lo que está en juego es la posibilidad de que mrs sea un verdadero vector de recuperación transformación

pero también es verdad que si la comunidad educativa ha superado este reto ha superado el tercer el primer trimestre ha sido sin duda gracias a la labor de todo el sector educativo

ingente que están haciendo profesionales familias y sobre todo el alumnado y digo esto porque creemos que en cuanto a medios personales y económicos que está facilitando el departamento de educación

están aguantando el tirón a duras penas tenemos que decirlo pero no sabemos cuánto más van a poder aguantar porque en medio de una pandemia en medio de una pandemia

pocos recursos económicos en las aulas y eso nos lleva entre otras cosas a tener a día de hoy

cerradas pero las partidas económicas no han subido para los centros el último ejemplo de cómo creemos que no se tienen que hacer las cosas lo hemos vivido aquí en gasteiz

iragarri zenituzten hogeita lau ordenagailuak ahora que la incidencia del covid ha golpeado y ha entrado más aun en las aulas ahora que el alumnado tiene que seguir

que a bombo y platillo anunciasteis puedes asegurarnos que todo el alumnado que lo necesita tiene ordenador y wifi hoy en día estando confinado

udalgintza pese a estar en medio de una pandemia la partida udalaguntza sigue siendo la misma

si arreglan la caldera de un centro si arreglan las ventanas de un centro

carpas en los centros pero da la casualidad de que pese a que las escuelas necesiten esas carpas pese a que las escuelas hagan peticiones a los ayuntamientos para instalar esas carpas

eskerrik asko presidente andrea me gustaría me hubiera gustado que el lehendakari estuviera presente en esta interpelación me imagino que la estará siguiendo desde alguno de sus despachos sobre todo porque es la mayor crisis

meses que lleva de gobierno y sobre todo porque por una cuestión como él mismo de honestidad rigor y transparencia al final le va a corresponder atajarla lehendakari y responsable máximo de este gobierno señora consejera va a seguir manteniendo que dice la verdad toda la verdad sobre este asunto

todo lo que ha pasado en relación a las vacunaciones irregulares y el papelón concreto del departamento de salud con usted a la cabeza y la dirección

es usted consciente de que parapetarse en una mera descoordinación es algo que no se va a poder mantener en el tiempo y que ello va a comprometer a todo un gobierno y al propio lehendakari que depositó su confianza en usted

un departamento que ya desde hace tiempo está cuestionado por la actuación

toda la verdad y que tiene todo el apoyo del gobierno además de las vacunaciones irregulares que usted sabe que ha faltado y sigue faltando a la verdad en sede parlamentaria todo lo que rodea a las vacunaciones señora consejera es un auténtico

criterios de vacunación que no están muy claros que le llevan a cambiar su protocolo el protocolo de folio y medio la planificación es un absoluto caos se empieza la fase de los sanitarios sin tener finalizada la fase del espacio sociosanitario porque usted sabe muy bien

no comprende solo el ámbito residencial sino centros de día discapacidad se empieza por la del resto de sanitarios

que empieza la del ámbito de la sanidad privada a esto hay que unirle todos los equilibrios territoriales que estamos conociendo que por cierto son muy llamativos

importante y suficiente que según usted pasa desapercibida como para vacunar a toda una plantilla decisiones

que se toman desde la arbitrariedad de forma descoordinada y sin ningún tipo de control

en definitiva señora consejera al margen de la verdad sobre su papel en las vacunaciones irregulares qué aspectos conoce de este asunto es que es obvio que usted ha faltado a la verdad todo en relación a la vacunación

como prefiera llamarlo usted está absolutamente inhabilitada

el departamento de salud por su descontrol la falta de transparencia

de todo el proceso de vacunación la gestión de las vacunaciones señora consejera

y no tiene un pase y usted como consejera de salud es la máxima responsable de este

aclarar las dudas que persisten en relación a las vacunaciones irregulares y si usted hoy por fin tiene a bien contestar o sigue sin contestar como es su costumbre

se producen el día tres en pleno puente de nochevieja de forma clandestina con nocturnidad con dosis sobrantes de las vacunaciones destinadas inicialmente

vamos a contextualizar bien este momento porque en ese momento no se había iniciado todavía el proceso de vacunación de los sanitarios los sanitarios

lo anuncia el día trece a la tarde precisamente después de una comisión en este parlamento en la que usted

el diecinueve de enero queremos saber si como usted ha dicho solo se vacunaron cuatro personas puede seguir afirmando que se vacunaron solo cuatro personas se vacunaron solo el día tres

quién organiza la vacunación y administra las dosis en un momento en que todavía no estaba montada la infraestructura

sanitarios es consciente del no registro de las vacunaciones y de que no constar un acto médico en la historia clínica de un paciente es un hecho de una enorme gravedad que roza lo delictivo y que podría rozar lo delictivo hablando de actuaciones presuntamente delictivas

va a incoar diligencias previas en este tema espero la colaboración

sea absoluta en este asunto usted mantuvo en comisión en sede parlamentaria que la técnica señora collazos

no se vacuna en ese momento pero sí se vacunó en un momento posterior en el momento

y por qué se vacuna y qué criterios se siguió para vacunación y la fecha del registro de esta vacunación nos puede decir también el día exacto en que se entera de las vacunaciones irregulares de basurto y cómo porque si se entera por la prensa quince días después desde luego

de los procesos de vacunación más de procesos irregulares que tenían que haber saltado las alarmas en su departamento y en la propia osakidetza hospital santa marina

ni de forma clandestina se hizo el día diecinueve cuando ya se había comenzado la vacuna en los centros sanitarios y en los profesionales de primera línea se hizo todo lo contrario y se hizo así

toda la plantilla o personal señora consejera estaba autorizado y se remiten para ello porque estaba autorizado vacunar a todo el personal o a toda la plantilla los cien viales necesarios

que se vacunaron finalmente todo estaba

y por la directora de osakidetza como ha quedado acreditado en los whatsapp que hemos tenido ocasión de conocer

que roza el carácter sociosanitario con muchos pacientes covid por lo tanto

podía haberse incluido y toda la ciudadanía lo hubiéramos entendido

no hubiera sido tan extraño señora consejera no cabe duda de que la vacunación de la totalidad del personal de la plantilla que engloba lo que engloba y usted muy bien lo sabe se hizo con su consentimiento y con su autorización por ello se vacuna su director

cómo se explica que el director de un hospital con la trayectoria que lleva este señor

es que no cabe en ninguna cabeza señora consejera y la vacunación como le decía es posible porque está autorizada y para ello se remiten los cien viales necesarios usted controla el envío de viales señora consejera cómo no va a controlar el envío de viales

escaso y enormemente demandado es oro señora consejera cómo usted no lo va a controlar y no controla el número de viales exactos que salen a las osi

un error muy grave señora consejera no una mera descoordinación como usted nos ha dicho por lo que usted debería no seguir al frente del departamento de salud nadie se cree que usted no supiera nada

correspondiera exclusivamente a la dirección de salud pública que depende de su departamento depende de usted misma y que en ese momento además estaba sin viceconsejero porque había dimitido la dirección de salud pública dependía en ese momento directamente de usted claro que autoriza la vacunación de santa marina por ello se remite

para grabar una vacunación que presentaba una particularidad respecto a otras vacunaciones que se estaban haciendo en otros centros hospitalarios y la particularidad era que se estaba vacunando todo el personal

de forma masiva además por cierto le venía muy bien para engrosar las cifras de vacunación muy cuestionadas en ese momento y esas cifras

incrementar las cifras de vacunación que eran muy escasas en ese momento otras preguntas señora consejera conoce usted más vacunaciones irregulares

como el departamento de salud por su incapacidad y por faltar a la verdad

nuestra osakidetza que es de todos no solo del pnv

y la última la suya y por una cuestión de honestidad de transparencia y rigor como dijo
usted se tiene que ir los ciudadanos y los profesionales nos merecemos un gobierno honesto transparente y que diga la verdad eskerrik asko garrido andrea

egun on creo señora garrido que estamos condenadas a no entendernos porque yo explico respondo

aquellas cuestiones sobre las que me pregunta o interpela y usted insiste en ignorar esas explicaciones

empezando por la justificación de la interpelación dicen ellas que las explicaciones fueron insuficientes ya que no tuvieron respuesta

yo entiendo que antes de mi comparecencia tuviera usted muchas preguntas que hacer pero esperaba que a medida que fuera transcurriendo la misma

contesté en segunda vuelta creo que a todas o casi todas

y me dispongo a hacerlo una tercera vez al menos aquellas que he ido apuntando

pregunta un miembro del comité técnico del labi se vacunó de forma irregular y clandestina ya dije en mi primera exposición quién se había vacunado

la jefa del servicio de enfermedades infecciosas y el director general pregunta suya

a esta a escondidas ya le dije que la vacunación de ese día la organizó

básica de prevención de basurto dado que la responsable estaba disfrutando de días de descanso

de osi bilbao basurto que había sido formado en la administración de

pregunta nos gustaría saber quién administró las dosis de esta vacuna también se lo dije el subdirector de enfermería de la osi bilbao basurto que había sido formado en la administración de la vacuna

incluso entre los centros residenciales que se vacunaron en la primera fase nosotros tenemos hospitales

pregunta procedimiento de asignación de las dosis a cada lugar de destino sencillo siguiendo las instrucciones criterios y prioridades establecidas las osi y organismos nos adscritos a osi solicitan lo que corresponda y desde los

se reparten de la forma más equitativa posible algo que

dada la disparidad de las estructuras de nuestra organización pregunta usted también está al tanto de la distribución de estas dosis no es a extremo de detalle esa semana sabe cuántas viales se repartieron dos mil setecientos lo que supone

pregunta cómo se enviaron ese número tan elevado de viales al hospital de santa marina porque se pidieron desde santa marina ya lo dije y también le dije

de que la cantidad solicitada no correspondía a las instrucciones facilitadas

estaba usted al corriente el señor sabas mantiene que tuvo conversaciones con usted

nos puede desvelar por favor el contenido de esa segunda conversación sí ya lo dice no fue una conversación fueron mensajes de wasap los leí pregunta usted consideró irregular el comportamiento del señor sabas al

ese era el objeto de la comparecencia que yo misma anuncié señalar un comportamiento irregular y explicar las medidas adoptadas pregunta usted cree que un director gerente de un hospital se vacuna anunciándolo a bombo y platillo grabándolo si considera que está haciendo algo a escondidas y sin la utilización debida eso no me corresponde a mí decirlo

se ignoraron unas instrucciones muy claras la gestión de un medio de comunicación interesado en la vacunación y el hecho de que se invitara se me invitara no tiene nada que ver con cómo tenían prevista y organizada la vacunación no tiene

estaba en la lista de vacunación y esperábamos que se hiciera siguiendo el protocolo establecido al efecto pregunta en relación a los criterios de residencias si el personal directivo se vacuna sí

es un hospital no una residencia no voy a insistir más en las preguntas que se van reiterando también en la interpelación de hoy como ve

antes de que se formulara y en mi primera intervención en la comisión del día veintisiete en la réplica y en la segunda réplica lo que veo es que

muchas más dosis de lo que correspondía no tanto el hecho de que el director

le recuerdo porque lo he dicho en muchas ocasiones que la exigencia de responsabilidades a los directores gerentes de los hospitales de basurto y santa marina se produjo

habiendo personas que sí lo son esperando su turno se vacunaran la solicitud de más viales

fue un incumplimiento de las instrucciones el envío de todo lo que se pidió un error de coordinación ninguna de esas razones es la causa

ya que insiste en preguntármelo como departamento de salud incluido osakidetza asumimos el error de coordinación

que asumimos y que hemos corregido mejorando los circuitos internos luego hemos asumido el error y hemos tomado medidas la falta

la verdad y además en sede parlamentaria y usted está obligada a decir la verdad

se lo preguntó también otra parlamentaria presente ahora mismo en esta sesión parlamentaria por favor que nos diga exactamente la fecha en la que se vacuna despeje las dudas en torno a esta cuestión cuándo se vacuna la técnico del labi qué responsable del área de prevención de basurto

si no tiene nada que ocultar y quiere decir la verdad dígalo mejor sitio que esta tribuna

representados todos los ciudadanos vascos dígalo dígalo en qué fecha se vacuna la técnico del labi

vamos a saber si estaba justificada esa vacunación pero dígalo aquí usted sabe perfectamente que santa marina es un centro no es una residencia ya sabemos que no es una residencia no hace falta

que no son sustanciales pero se asemeja a un centro de carácter sociosanitario por el número de pacientes covid que tiene por el número

a estos pacientes por la edad de los pacientes por lo tanto si se hubiera procedido a la vacunación

aunque no sea un centro residencial que ya lo sabemos señora consejera que ya lo sabemos no hubiera sido descabellado el problema está que usted autorizó

para vacunar a todo el personal y la plantilla y eso queda perfectamente acreditado en los wasaps que usted intercambia con el director gerente del hospital y la directora general de osakidetza es que la directora general a usted se le informa de que se está vacunando la totalidad de la plantilla les están informando

y cuando la directora general le dice que si se ha vacunado toda la plantilla él dice que sí y le desglosa las categorías y le detalla ese personal ella le pregunta expresamente si el equipo también está vacunado

y esa decisión de vacunar al personal directivo hubiera sido tan chocante y hubiera sido irregular

claramente cuando le dicen la totalidad del personal es que se lo dicen varias veces es que se lo dicen varias veces usted no cuestiona y no

cuál es la totalidad del personal usted no plantea dudas pero porque usted ya sabe cuál es la totalidad del personal pero es que además se envían los viales exactos señora consejera cómo puede ser posible que en ese momento

donde sabemos lo que es un vial un vial es un bien absolutamente escaso es oro es lo más preciado en este momento usted no sepa los viales que se mandan a los osi y a las distintas organizaciones sanitarias ni a los distintos hospitales en este caso santa marina cómo es posible ese descontrol señora consejera

por una cuestión como le digo de honestidad y rigor y transparencia como dice el lehendakari porque al final si no usted va a estar comprometiendo a este gobierno

y tiene un absoluto descontrol del proceso de vacunación usted no está capacitada para seguir al frente del departamento de salud es que estamos hablando de cuestiones muy graves estamos hablando de la salud de todos nosotros estamos hablando de acabar con esta pandemia

mientras los viales están repartiendo sin control de forma descoordinada y la consejera no sabe

usted sabe perfectamente a dónde van los viales claro usted dice

que usted haya podido hacer dimitir al director gerente de un hospital por una actuación irregular que usted pudo autorizar claro que me preocupa

al director gerente del hospital usted se tiene que ir con él usted se tiene que ir señora consejera

dimitir a una persona que ha hecho una conducta irregular y usted lo ha tolerado
usted no puede seguir un minuto más al frente del departamento de salud eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

la responsable de la unidad básica de prevención de basurto de basurto se vacunó el día quince

inició la vacunación para profesionales y en función de qué en función

mire lo único que puede concluirse de las publicaciones habidas entre

general de osakidetza con el exdirector gerente de santa marina es que no se sabía que la vacunación estaba siendo

usted defiende la postura del señor director de santa marina de que se vacunara parece porque no hay otra forma

la directora si se ha vacunado la dirección y si las vacunas

o simplemente se les había asignado y el tema las respuestas son tan graves que otras cosas no se resuelven por pasar se resuelven

y eso es lo que al día siguiente hizo la directora general

trasladarse a basurto y trasladarse

para hablar con los directores gerentes de cada uno de los centros

gerencia de un hospital se considera como cargo directivo sujeto al régimen del artículo veintisiete de la ley ocho de mil novecientos noventa y siete

así como lo dispuesto en la ley uno de dos mil catorce de veintiséis de junio reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos

gerencia se efectuará por la dirección general del ente público

capacidad y experiencia profesional para el desempeño del cargo

por su parte será discrecional pero la resolución

corresponde a la dirección gerencia entre otras muchas funciones aprobar de acuerdo con los criterios establecidos por el consejo

las normas y criterios de carácter organizativo aplicables a los distintos servicios que conforman la osi y en este caso los hospitales

los intereses y las responsabilidades de cada director gerente no empiezan ni terminan en la organización que lidera para nosotros y nosotras son parte de nuestro equipo directivo de osakidetza y deben ver y velar

no pueden ignorar que pidiendo dosis para todo su hospital y que cuando realizan la vacunación en un solo día no en tandas y cumpliendo los protocolos escritos

la vacunación de otras personas en otros centros que están atendiendo también en primera línea a enfermos covid no hay razón alguna

lo hubiéramos consentido razón alguna esan bezala

eredugarriagoa izan behar dutelako pero si hemos llegado a este punto

es porque se perdió la confianza en unos altos responsables de osakidetza

haber tenido un comportamiento más ejemplar acorde con la actual escasez de vacunas para atender a todas las personas vulnerables o a las personas expuestas al contagio en los propios servicios sanitarios eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todos y todas

de salud antes que nada le pediría que entregue al lehendakari

de pensilvania en su respuesta a una petición de mi grupo para conocer los lugares en los que se registra la mayor parte de los contagios por covid diecinueve en el país vasco

un informe elaborado por la universidad de pensilvania no por sus rastreadores

pensilvania la guía del gobierno vasco para decidir qué actividades limitar cuales cerrar y si usted no lo tiene se lo entrego yo no hay problema lo tengo aquí guardado

en ese caso este sería un fructífero pleno de control y no solo un intercambio de golpes entre la oposición y el gobierno pero desconfío después de lo que he escuchado

la semana pasada estuve comentando todo este asunto del protocolo de vacunación con una amiga periodista

ausencia de autocrítica en su gestión con lo que estamos sabiendo me decía y ambas concluimos que es hasta

apenas un par de folios con vagas indicaciones interpretables como el más confuso texto legal

realmente existe su protocolo le hemos escuchado en repetidas ocasiones hablar de él pero saltó a la luz cuando supimos que en el hospital de basurto el director gerente se lo había saltado para vacunarse de los primeros

otra situación un auténtico problema para usted pero

allí se había vacunado toda la plantilla algo jamás contemplado en ese protocolo suyo del que seguimos sin conocer los detalles

creo que si nos explican que en el hospital con más casos del covid diecinueve el riesgo que corren todos los profesionales que allí trabajan pocos seríamos quienes nos opondríamos a que realmente se vacunasen en lugar de ello

apenas ocupaba dos folios y por lo visto además interpretables es más para resolver las dudas el gerente del hospital josé luis sabas

tenemos cien viales y nos vamos a vacunar todos podemos llamar a los medios

leído no es realmente lo que hemos leído por cierto una cuestión que ya le planteé y que no tengo clara del todo porque no me la respondió también para esta gente se ha reservado la segunda dosis de la vacuna

ha sido inoculada de forma irregular no ha lugar a la segunda pero también hay quien prioriza el criterio más sanitario para considerar que iniciado el proceso lo mejor es concluirlo como se debe no sé qué dice su protocolo

sí parece que alude espejo de aquel que elaboró el ministerio de sanidad a personas residenciadas trabajadores de residencias profesionales de primera línea

y nada más el resto de colectivos y personas que a buen seguro deberían estar ya incluidos en estos protocolos muy desarrollados y con listados muy precisos

estoy convencida de que cualquier administración seria tiene avanzados ya sus protocolos más allá de las personas mayores de setenta años no imagino a las autoridades alemanas sin tener la más mínima idea de quién vendrá después de quién quien irá antes de quién pero aquí todo son incógnitas imaginamos

a saber en qué orden pacientes crónicos con enfermedades graves pacientes crónicos en general trabajadores esenciales eso sí una vez nos haya aclarado cuáles lo son y cuáles no ya que al principio de la pandemia por ejemplo las peluquerías eran servicios esenciales ahora parece que no

panaderos comerciantes conductores de autobús transportistas

también tienen derecho a inmunizarse contra ese virus que nos ha cambiado la vida un listado interminable que ustedes deberán ordenar si es que no lo han hecho ya

a qué esperan al momento propicio para ustedes y ya que hablamos de colectivos concretos cómo explica esa variación más que notable del porcentaje de profesionales vacunados

cómo explica que sean muchos más los vacunados en cruces que en basurto por ejemplo qué dice su protocolo acerca de esta cuestión y supongo que también tendrán claro que hay que vacunar a esos profesionales no integrados en osakidetza pero que prestan servicios en primera línea como médicos y enfermeras hablo de la vacunación de profesionales de la sanidad privada también expuestos como los de la pública a la covid hemeretzi

que la toma de decisiones y la adopción de medidas es muy compleja que su papel es muy comprometido pero es el que ustedes han elegido tener y por el que han de responder y esto me lleva a otra duda que tal vez tenga a bien resolvernos hoy con quién cuenta usted para diseñar el protocolo para detallar el listado para concretar la forma de citación

el registro de cada persona inmunizada la formación de los profesionales asusta pensar que sus asesores expertos sean las mismas personas que conforman el labi de quienes ya nadie duda de un marcado perfil político muy cercano a este gobierno y que relegan a un segundo plano los criterios sanitarios

estos días estamos oyendo también a muchas personas expertos y no tanto hablar de vacunas de protocolos de vacunación de si tal o cual vacuna es más efectiva que las otras si esta se conserva mejor o peor si aquella es más cara que esta si esta inocula el virus y la de más allá los anticuerpos

y ustedes desde la administración refuerzan esta confusión parece ser el terreno en el que mejor se manejan pero esos mismos expertos insisten en que lo mejor es

los tiempos previstos las dificultades a sortear nos dijeron en el mes de diciembre que en verano estaría vacunado el setenta por ciento de la población vasca pero al ritmo que vamos con poco más del dos por ciento en un mes no me parece probable alcanzar la inmunidad de grupo antes del dos mil veinticuatro

usted ha cambiado el discurso para anunciarnos que tan ansiada inmunidad se conseguirá lo antes posible de la manera más eficiente y ordenada posible

política del siglo veintiuno palabras vacías que parecen significar algo pero que no dicen absolutamente nada una cortina de humo nada

pues bien hoy tiene una magnífica oportunidad para concretarnos un poco más ese lo antes posible y detallarnos esa manera más eficiente y ordenada posible porque hasta ahora lo que sabemos es que su protocolo ese que ocupa dos folios y se discute por whatsapp

porque hemos podido comprobar que su sistema de vigilancia hace aguas por todas partes algo falla y usted lo sabe y yo sé por experiencia que hoy ni va a reconocer fallo alguno ni siquiera nos va a contar la verdad todo ello en un escenario en el que la transparencia cobra una especial importancia

más aún quienes están amenazados por la ruina quienes ya viven en la ruina quienes hoy abren mañana cierran y vuelven a abrir pero a medias esas miles de personas que empiezan a perder toda esperanza de recuperar la vieja normalidad su querida normalidad

del proceso por su evidente carencia de la más elemental estrategia porque se intuye de nuevo esa improvisación de la que han hecho gala desde el inicio de la pandemia porque sabemos que no nos cuenta toda la verdad

de datos de que usted dispone de datos mis preguntas son qué previsiones manejan ustedes en lo que al número de vacunas disponibles se refieren qué tipo de vacunas son las que ustedes van a inocular y a qué colectivos concretos

ustedes el de verdad no el de su discurso político qué colectivos prioritarios han identificado ustedes y cuál es el orden previsto de vacunación de las personas que la integran

y una pregunta aún más inquietante de verdad tienen protocolo eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza

dije la verdad estoy diciendo la verdad y seguiré diciendo la verdad usted

lo siento pero la verdad es la que yo les

en comisión y hoy nuevamente les relato pero voy a la interpelación que plantea el grupo mixto una cuestión muy concreta

a comentar porque no puedo pasarlo por alto algunas de las consideraciones que hace la justificación de su interpelación y que también ha mencionado

el protocolo al que se hace referencia tiene notables lagunas le falta mucho desarrollo en aspectos como el horizonte temporal que se prevé para la obtención de determinados objetivos y las prioridades de vacunación de colectivos concretos de personas cree usted

imposible tener una idea aproximada que el ejecutivo vasco baraja para lograr la tan ansiada inmunidad de grupo siento que las comparecencias semanales le hayan servido para tan poco de verdad tanto a usted como a mí

ez da gaitasuneko arazo bat txertoen eskuragarritasunekoa baizik ninguno de los protocolos actualmente en vigor para el proceso de vacunación tiene horizonte temporal alguno ni el del ministerio de sanidad

y presumo no lo sé seguro que ninguno de los ejecutivos que ustedes apoyan en otras comunidades autónomas si alguno ha sido capaz de decir cuándo tendrán

me lo pasara no sabemos cuál va a ser la disponibilidad de vacunas la medida en la que se lo vamos contando además y no tenemos horizontes temporales más concretos que vayan más allá de las residencias y del personal sanitario

los plazos de vacunación dependen de la disponibilidad de vacunas le recuerdo que ha sido la unión europea quien ha centralizado y asumido la compra de vacunas

recibimos igualmente la cantidad que corresponde a euskadi de forma equitativa

hasta la fecha solo hay tres vacunas aprobadas y serios problemas de producción y cumplimiento de compromisos de entrega por parte de las farmacéuticas lo que si no se tiene estrategia pone en grave peligro la inmunidad que han adquirido la primera dosis le recuerdo que en euskadi eso no es así tiene dudas sobre la existencia de estrategias y protocolos

existen dos básicos y le aseguro que tienen más de dos folios solo hay que consultarlos yo se los facilito me he referido a ellos en más de una ocasión

grupo de trabajo técnico de vacunación covid diecinueve

aquí están las comunidades el ministerio asociaciones profesionales su primer documento es el de dos de diciembre de dos mil veinte actualizado el diecisiete de diciembre y el veintiuno de enero de este año

junto con representantes de las comunidades de andalucía canarias cataluña valencia galicia

y en su página cuatro dice en función de la disponibilidad de dosis de vacunas repito en función de la disponibilidad de dosis de vacunas la estrategia establece tres en la primera etapa

uno residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaje en residencias de personas mayores y de atención

dos personal de primera línea del ámbito sanitario y sociosanitario tres otro personal sanitario y sociosanitario

es decir con necesidades intensas de medidas de apoyo que no estén institucionalizadas

indica que se irá actualizando a medida que se vaya disponiendo de información

está en continua revisión a partir de información sobre las vacunas que están en evaluación en la agencia europea de los medicamentos

después de una descripción más exhaustiva sobre el personal sanitario y sociosanitario continúa el documento diciendo por lo tanto

para vacunación a la población más vulnerable y más expuesta se comenzará a vacunar al grupo de población de más edad es decir

personas mayores de ochenta y más años no de setenta de ochenta y más años

está condicionado desde el inicio a la disposición

más breve porque ya se dispone de una referencia el anterior

por ejemplo después de describir la preferencia entre colectivos de personas que trabajan en los centros de salud incorpora cuestiones muy importantes para la prevención

en la fase inicial de la vacunación de una parte de cada servicio o unidad no sobrepasar el cincuenta por ciento mantener un rango entre un tercio y la mitad de los efectivos

registro vacunación propiamente dicha campaña informativa casos especiales aclaraciones y puntualizaciones saben que existe este documento

actualizando en función de la situación en función de la tipología de las vacunas

queda supeditado a la disponibilidad de las mismas dice que es imposible tener una idea aproximada que el ejecutivo vasco baraja para lograr la tan ansiada inmunidad de grupo hemos venido diciendo

fechas para tal cosa y no lo haremos porque no queremos generar falsas expectativas a la ciudadanía

responde a su pregunta vacunación depende de la disponibilidad de las vacunas

aún para otros colectivos no en euskadi no lo hay en ningún sitio y voy a responder a algo que sí he respondido

administración de la segunda dosis a los gerentes del hospital de basurto

de ambos centros hemos dicho desde el inicio se trata acto médico se trata de garantizar
las personas nosotros eso no lo vamos a poner en riesgo eskerrik asko eskerrik asko

no habló dice de horizonte temporal sí que lo habló habló acuérdese en mi primera intervención le he dicho que este podría ser un gran día si de aquí saliesemos todos con más información acerca de sus planes para vacunar a la población vasca para alcanzar la inmunidad de grupo podría ser un gran día si sus respuestas

el final de este calvario que estamos viviendo desde hace ya un año pero no

nos acostamos sabiendo lo mismo que sabíamos al despertarnos bueno he de reconocer que hay días que nos metemos en la cama con más dudas de las que teníamos al desayunar me voy convencida

y si lo tienen es un hecho que no quieren enfrentar el difícil momento de dárnoslo a conocer a nosotros y a toda la ciudadanía que tiene además depositadas sus esperanzas en la vacunación y esta falta de transparencia y de compromiso con la ciudadanía para la que dice trabajar solo esto

más desacreditada aún al ser su responsabilidad una de las más sensibles en este difícil momento que nos está tocando vivir que a usted le ha tocado gestionar es un motivo más para pedirle que dimita para pedirle al lehendakari urkullu que la cese para rendir cuentas ante la sociedad

asuma sus responsabilidades y dé ejemplo a una ciudadanía que necesita confiar que necesita creer que su futuro está en buenas manos a la que le urge

a día saben lo que hacen y tienen las manos limpias es más a esta flagrante falta de transparencia a este constante ejercicio de opacidad se le suma el innegable ejercicio de la mentira en sede parlamentaria

sus falsedades han soliviantado a todos los representantes de la oposición

opacidad mentiras evidente imprevisión e improvisación falta de compromiso seguidismo de criterios políticos en detrimento de los sanitarios que deberían además imperar en la gestión de esta crisis nula

y ni atisbo de autocrítica han sido constantes del ejercicio de su cargo desde el pasado mes de septiembre y a todo ello hay que sumar los datos de la pandemia

semanas con servicios hospitalarios cada vez más saturados consecuencia

las mismas que no han conseguido frenar el ritmo de contagios que han condenado repito a la ruina a miles de pequeños empresarios y autónomos a la pobreza

albergo un escaso optimismo de que esto vaya a ocurrir

han demostrado que en castellano no saben conjugar los verbos dimitir y cesar sabrán hacerlos en euskera muchas gracias eskerrik asko martínez

y lo saben usted menciona el horizonte del verano le recuerdo que

de vacunas sí ese era era la planificación de compromiso de entrega de vacunas por parte de las farmacéuticas

cómo se estaba produciendo su adjudicación cómo solamente había una establecimos una estrategia una estrategia que garantizaba

pero no eso no lo quiere escuchar pero mire no

la preocupación de la ciudadanía con esta situación aventurando fechas ni creando ilusiones

ni el estado español ni europa pueden prever ni europa

de las contrataciones de las vacunas puede prever no lo hicimos

de administración de vacunas y no lo vamos a hacer

y está visto no hay ahora garantías de suministro de vacunas constante en otros lugares esto está creando problemas

exactamente como establecen las fechas técnicas de las vacunas

podemos garantizar la segunda dosis de ambas vacunas que se están administrando hasta ahora

y seguir administrando primeras dosis aunque haciendo ajustes diarios y semanales y eso ahora ya no es relevante no es relevante

procesos de inmunización euskadi está en disposición de vacunar todo lo que nos llegue desde la unión europea vacunamos casi seiscientos mil personas de la gripe en dos meses si fuera necesario

podríamos poder administrar tal cantidad de vacunas a fecha de hoy se han administrado

veintiuno mil seiscientos treinta y cuatro dosis segundas dosis de ellas

en personal sanitario y trescientos trece segundas dosis en personal sanitario el veintinueve por ciento de la plantilla

y tenemos que seguir garantizando las segundas dosis

y un protocolo que estamos cumpliendo por eso lo podemos hacer y eso se llama

yo le voy a liberar unos minutos señora consejera del tema de las vacunas

y sobre todo que a miles de vecinas y vecinos en este caso de bilbao pero también de otras localidades de euskadi

preocupados y cabreados como usted recuerda hace dos meses

cuestión les escuchamos y le instamos en aquella ocasión le pedimos que rectificasen lo que en nuestra opinión es una decisión que debilita

y que tiene unas afecciones negativas en la ciudadanía en este caso de bilbao a nosotros

entiendo que ustedes han seguido para adelante con esta decisión de cerrar el horario nocturno del punto de atención continuada

de deusto en la atención presencial y en este tiempo pues miles de vecinas

los trabajadores de osakidetza asociaciones en defensa de la sanidad pública incluso

les ha venido reclamando la misma cuestión les ha venido a ustedes intentando explicar las razones la importancia del porqué no cerrar el horario nocturno presencial de este punto de atención continuada

en su decisión usted sabe que nos parece una decisión totalmente errática entiendo que no nos haga caso a nosotros pero sería deseable que escuchase

una buena oportunidad para repensar esta cuestión y decidir mantener

si creen ustedes que realmente es una buena decisión

este horario en el punto de atención continuada de deusto más en esta situación de pandemia que tenemos en estos momentos eskerrik asko

presidente andrea eskerrik asko en primer lugar creo que no sé si lo mejor pero desde luego si es bueno no confundir a los vecinos y las vecinas de deusto y a la población en general

el punto de atención continuada en deusto es verdad que en una de sus menciones ha dicho presencial pero lo demás y así está formulada la pregunta hablan de cerrar el punto de atención continuada de deusto y no se cierra el pac se mantiene y su servicio también se mantiene

lo que se modifica es la forma de prestar el servicio entre las cero horas y las ocho de la mañana

ciudadanía que necesita atención durante ese horario en lugar de trasladarse al centro llama telefónicamente al mismo y puede solicitar

en su domicilio el servicio se mantiene y además

digámoslo digamos que es así no que se cierra y además

estamos en una situación de pandemia no le parece mucho más

en la atención primaria en lugares y horarios en los que más demanda hay

en el que la media de personas que acuden al centro en esas ocho horas
cero y las ocho de la mañana no llega a cinco personas eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera creo que la que continuamente pretende confundir es usted usted y yo

sabemos perfectamente de lo que estamos hablando tanto hoy como hace dos meses yo me he referido al horario nocturno en atención presencial

hay que decirlo con todas las palabras señora consejera tengo cuatro minutos y sabemos de lo que estamos hablando y sobre todas las vecinas y los vecinos de bilbao saben de lo que estamos hablando la cuestión es

o no es una buena decisión y ustedes sostienen que es una buena decisión y además argumenta que es una cuestión pues de reorganización incluso que es mejor

me apela a que hay que elegir entre horarios no hay que elegir entre horarios la atención nocturna es un servicio

y que es positivo y que sabemos que mucha gente con muchas patologías que consideramos

de la calle que a veces consideramos que no son tan graves como para ir a unas urgencias hospitalarias en la atención cercana en la atención primaria acudimos y cuando se cierra vamos a dejar a mucha gente sin la asistencia que deberían haber tenido

mucha gente no va a acudir y además es contrario

la importancia de los puntos de atención continuada la cercanía de la atención primaria no saturar las urgencias hospitalarias y este tipo de decisiones van en contra de eso

señora consejera nosotros les pedimos una vez más que rectifiquen esta decisión y concentrar a la gente en urgencias hospitalarias sean ocho más o sean veinte más es una mala decisión cuando estamos diciendo también a la gente
que evite las aglomeraciones y concentraciones eskerrik asko hernández jauna

pero que lo ha dicho usted otra vez que se mantiene la atención nocturna yo primero me remito

segundo luego cuando habla del discurso dice que no mantenemos la atención durante ese horario y es que sí se mantiene esa atención es más se ofrece esa atención a domicilio

antes le he dicho una media de cinco pero le voy a aportar algunos datos voy a olvidarme del año dos mil veinte porque lo que se refiere a la demanda y a la atención sanitaria ha sido totalmente atípico pero por ejemplo en noviembre de dos mil diecinueve

ni periodos de vacaciones de las ciento treinta personas que acudieron en horario nocturno solo eran de deusto cuarenta y dos de deusto

cuarenta y dos el resto eran de otros barrios o de otros pueblos incluso de bizkaia del total de los pacientes atendidos en horario nocturno

al día siguiente por su médico de cabecera lo que nos da una señal de la patología no se puede concluir que más que el noventa por ciento

pluripatológicos crónicos que pueden tener circunstancias comprometidas

luego no fuera considerado como un proceso grave

mantener el pac abierto desde medianoche hasta las ocho de la mañana exige la presencia durante todo ese tiempo de tres personas personal médico personal de enfermería y personal administrativo tres personas cada una de ellas para recibir a menos de cinco personas lo dije en la anterior sí y vuelvo a decirlo lo dije en el anterior periodo de sesiones y lo tengo que decir

realizar un mayor desplazamiento por ejemplo hasta el hospital de basurto es un valor que pueda justificar mantener el servicio en las actuales circunstancias es necesario priorizar y además

durante ese horario de cero a ocho de la mañana luego la atención está garantizada y es el propio personal del pac el que lo hace en esa atención a domicilio que no está además

porque la media de personas usuarias no alcanza a una persona y por otro porque las urgencias del hospital de basurto en esa franja horaria de media

menores como es evidente este servicio tiene capacidad

y puede atender aquellos procesos que requieren de su participación luego la atención sanitaria al barrio de deusto a la ciudadanía que accede a ese ambulatorio está también garantizada
y con toda calidad le vuelvo a insistir eskerrik asko sailburu andrea

epidemiologikoa soilik euskal egoitza arretaren ereduarekin estuki lotuta baitago esto es lo que nos preocupa realmente el modelo que ustedes señora artolazabal

es el modelo de las dos p privatización y precariedad

como un negocio y les parece una idea brillante dejarlo en manos del mercado pero sabe qué les décimos que el cuidado no es un bien de consumo sino de vida

muerte necropolítica que se llama esto

y no estamos en la primera ola y ya no hay errores ni cálculos mal hechos

la actuación de las administraciones públicas y del gobierno vasco concretamente están siendo negligentes no se trata de que no sepan qué tienen que hacer se trata de que aun sabiéndolo no lo hacen zer egin behar den jakinda ere ez duzuela egiten supongo que nos dirán que la más adecuada para interpelar sobre este tema sería a la consejera de salud

pero le interpelo hoy a usted porque nos preocupa que se sigan abordándose los brotes y la imposibilidad de controlarlos sin mirarlos desde el modelo de servicios sociales que tenemos zu eta zure saila funtsezkoak dira

falta coordinación interinstitucional y mecanismos de control entre los departamentos de salud y de políticas sociales y así nos va se pasan la pelota entre administraciones de una ventanilla otra

no protesta por vicio protesta porque la están explotando

pero es que nos parece urgente la respuesta debe venir de la acción conjunta y coordinada señora artolazabal mire

no consigo ver esa coordinación eficaz desde su departamento eta ez dizut esan nahi

hoy le hablo de las residencias porque es donde estamos viviendo el impacto más sangrante del sistema y bueno nos están pidiendo medidas de refuerzo

desde la teleasistencia el tercer sector también que se carga con la responsabilidad

y aquí va nuestra interpelación queremos saber qué medidas se están poniendo en marcha desde su departamento en coordinación con otros departamentos para proteger a las personas de las residencias a las residentes a las trabajadoras

protección eficaz para que el bienestar de nuestras mayores esté a la par en importancia que las restricciones a la movilidad por ejemplo para que las trabajadoras cuenten con información adecuada sobre la repercusión de vacunarse o tengan confianza

y se ponen en marcha refuerzos a su trabajo porque no pueden volver a pasar por el sobreesfuerzo de la primera ola sabemos que va a seguir habiendo contagios y que la saturación de los hospitales va a seguir aumentando que va a aumentar

es que somos conscientes de que estamos en una pandemia pero lo que no vamos a aceptar es la necropolítica a cambio sobre todo de ganancias económicas
o de descoordinaciones eskerrik asko

izan dira durante estas últimas semanas han surgido algunos brotes en el ámbito residencial como usted decía estos brotes son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad vasca

gracias a la experiencia acumulada durante tantos meses de pandemia en este largo año las instituciones vascas hemos estado preocupadas y ocupadas en mitigar las consecuencias de la pandemia en nuestras residencias

ha sido la colaboración y coordinación entre el gobierno vasco y las diputaciones forales como usted misma reconocía necesaria en la justificación de su interpelación con el departamento de salud al frente y con el apoyo del departamento de igualdad justicia y políticas sociales

ante una situación tan grave importante señora gonzález coordinación y colaboración entre todas las instituciones también con el ministerio de políticas sociales

una cosa que a mí me parece que es importante y a tener en cuenta nos consta que los mecanismos asistenciales han funcionado en euskadi se observó un gran esfuerzo de las residencias por implementar y respetar los circuitos y las medidas de prevención y control de la infección propuestas en euskadi

en la implementación de decisiones no como en el caso de otras comunidades autónomas donde hubo poca colaboración entre instituciones dependiendo de quién las gobernara

ni esta consejera le he leído literalmente párrafos de una carta firmada por la doctora di loio como responsable de intervención a mayores de médicos sin fronteras

en relación al informe al que usted alude sobre la situación que se ha dado en las residencias en el estado y es esta carta en barcelona diecinueve de agosto si quiere luego podríamos hablar de este informe quiero recordarle también que en euskadi nos hemos dotado

en la gestión de estos centros aparteko egoeretan ezohiko erantzunak

bestelakoa en situaciones extraordinarias

estrecha y directa con salud para permitir abordar esta situación

y había que adecuar además la gestión de los centros de competencia foral a la situación de pandemia y es lo que hemos hecho desde un primer momento se aprobaron planes de contingencia en las residencias vascas esos planes de contingencia se aprobaron en las residencias

por cierto esta es una de las recomendaciones que aparecen en el informe al que usted alude en su justificación y además se ampliaron los equipos de inspección de centros residenciales con personal mixto tanto de los servicios forales de inspección como del departamento de salud siendo esta una medida pionera en el estado y puedo afirmar con rotundidad que el sistema ha funcionado correctamente a pesar

porque el decreto de residencias aprobado en el año dos mil diecinueve contemplaba ya la mayoría de las recomendaciones recogidas en ese informe al que usted alude de médicos sin fronteras

establecer unas condiciones mínimas en el área sanitaria obligatoria una atención personalizada un modelo de calidad de vida de calidad en la gestión de ética en la intervención

regulado por el decreto aprobado a mediados de dos mil diecinueve no tiene nada que ver con la situación descrita en el informe de médicos sin fronteras

que en euskadi no ha prosperado ningún intento de judicializar la atención en las residencias porque una cosa es el modelo de residencias

la provisión del servicio de las residencias en el marco de esta tercera ola el gobierno sigue intensificando sus esfuerzos en vacunar a todas las personas de las residencias tanto

y dar mayor seguridad a las familias y desde la mayor prudencia posible

en este contexto la dirección de servicios sociales y la viceconsejería de políticas sociales ha estado trabajando intensamente y nos hemos centrado también en otros aspectos claves para atender esta situación la adecuación de los servicios que forman parte de la acción directa del gobierno vasco en la situación de pandemia

ha dado respuesta a las familias incluidas las que tenían familiares en residencias que han perdido a un ser querido como consecuencia del covid sin poder realizar un duelo normal desde el departamento hemos transmitido también protocolos y pautas de actuación

general del estado para distintos servicios y ámbitos así como en general la canalización de la información y la transmisión de las necesidades observadas en base a esa coordinación entre instituciones y también con el departamento de salud

por otro lado también hemos mantenido la dinámica de la coordinación propia del sistema vasco de servicios sociales y la coordinación sociosanitaria

de servicios sociales y el consejo vasco de atención sociosanitaria han sido muchas las ocasiones en las que hemos debatido y compartido reflexiones relativas al modelo de residencias en euskadi y no es verdad señora gonzález su afirmación de que las personas usuarias de las residencias han estado desamparadas

se han tomado decisiones difíciles en momentos muy complicados y quiero avanzarles también algunas de nuestras intenciones de cara a futuro que de hecho forman parte de nuestra planificación

y esta adecuación forma parte también de un objetivo mayor y más complejo como es el de abordar un modelo de cuidados en su amplia expresión en esta revisión tomaremos en consideración aprendizajes derivados de la crisis sanitaria

de alternativas residenciales en función de las necesidades

que el decreto en vigor ya contempla sin perjuicio de que puedan actualizarse o mejorarse aspectos en este sentido un decreto que perfeccionaremos para mejorar

pero preservando el carácter social de los mismos y en segundo lugar vamos a necesitar también repensar las alternativas intermedias entre los centros residenciales

a reforzar de acuerdo con el deseo expresado por las propias personas mayores nuestro objetivo señora

reforzando la atención a las personas que residen en el domicilio desde la atención primaria y secundaria y voy concluyendo esta primera intervención esta semana pudimos

experto en un medio de comunicación en euskadi que decía que euskadi invirtió en protección social veinte mil millónes de euros en dos mil diecinueve

debemos recordar que en este momento el gasto corriente público solo en centros residenciales para personas mayores representa en torno al treinta por ciento del gasto corriente público en el sistema vasco de servicios sociales estamos dedicando casi

y como ve señora gonzález estamos y vamos a seguir estando coordinándonos con el departamento de salud y con las diputaciones forales coordinación con el objetivo

para evitar las consecuencias dramáticas que han sufrido muchas familias en euskadi y concluyo con la afirmación de la intervención de médicos

que no es el gasto que es el modelo que es que no es el gasto por persona que es el modelo el modelo de cómo lo gastamos arretaz entzuten dizut

bikain funtzionatuko balu bezala egia absoluta balitz bezala zintzoa izan mire baños de realidad turno de noche una trabajadora de una residencia cuarenta personas

piden revisión de ratios porque no llegan pero ustedes ni caso

por usuaria cuando lo recomendable son dos horas en las residencias

euros brutos al mes una miseria con las trabajadoras señora artolazabal no están coordinadas cierran el servicio a las personas mayores dependientes de la residencia de gallarta cierra los pac el de deusto por ejemplo que han estado hoy aquí

de sesenta y cuatro plazas públicas en residencias y esto se traduce en más privatización y más desplazamientos para enfermos y familiares

los servicios sociales progresivamente hablan de la persona en el centro de no dejar a nadie atrás y lo que vemos es que eso es vacío de contenido es retórica política pura y dura y también suma y sigue

de las residencias tampoco con las familias ni con las usuarias con quién se coordinan

y ver qué condiciones son necesarias para reforzar qué medidas deben tomarse cuáles son las que no están siendo efectivas orain inoiz baino gehiago gizarte zerbitzuen plan

zer funtzionatzen duen eta zer ez y seguimos sin dotarnos de una cogobernanza real ni efectiva sin apostar por lo público y lo comunitario y aquí basta con mirar rápido la economía para los cuidados del plan

basta con mirar los presupuestos de su departamento misma inversión para el fondo de cartera de verdad es que no se consideran más plazas necesarias más plazas públicas

de por qué no se consiguen frenar los brotes y debería usted estar ejerciendo ese liderazgo y su departamento también eredua

bueno y no es a nosotras a quien nos hace daño esto

es a las personas a esas personas a las que el sistema tiene la obligación de velar por su derecho a la protección social porque nos estamos dejando a la vez que damos la espalda a lo que todos esos informes de lo que usted mencionaba y que nosotras también conocemos señalan

y que la desigualdad sí condiciona su impacto arrakala soziala genero

eragin negatibo handiagoa izateko no vamos a renunciar a seguir luchando por este cambio de modelo

que actúe en aras de reforzar los servicios sociales hay que implementar los protocolos covid y los protocolos de vacunación

en ello y porque ahora no podrán ampararse en que no sabían a qué se enfrentaban se les están acabando las excusas para seguir inmóviles y yo le digo no se quede inmóvil en el camino señora artolazabal

eskerrik asko mahaiburu andrea señora gonzález soy consciente de los momentos difíciles y especialmente duros que se han vivido en las residencias vascas

no seguimos inmóviles sino que estamos trabajando trabajando desde la coordinación

para poder dar un servicio de calidad en unos momentos tan difíciles

intensa no solamente el departamento de políticas sociales sino también las diputaciones que son las competentes en su gestión y desde luego con el liderazgo del departamento de salud

y el objetivo de toda nuestra actuación y para eso se han ido poniendo encima de la mesa diferentes planes de contingencia diferentes medidas que han evitado males mayores se produjeran en esas residencias

se inició la pandemia que hemos avanzado y mucho y además esa experiencia nos va a ayudar a poder seguir mejorando hemos aprendido y también todo

y creo que la situación es una situación favorable en relación a la situación de pandemia tan dura que hemos vivido gracias al modelo del que nos hemos dotado porque lo decía en mi primera intervención

para nosotros es un modelo válido para proteger a las personas y garantizar los servicios y los derechos que tienen pero lo que ustedes siempre están planteando es el modelo de gestión de dichos servicios lo público frente a lo privado y en ese debate en esa discusión

dos puntos de vista totalmente diferentes ustedes solo quieren un servicio público y nosotros abogamos por un servicio público público compartido desde el punto de vista

del tercer sector porque creemos que es un modelo que enriquece y que sí que está dando resultado ante las situaciones tan complicadas a las que nos hemos enfrentado y además que este modelo

y tenemos ejemplos fehacientes de su éxito

en establecer planes de contingencia para la atención a las residencias y al resto de servicios incluidos en el sistema vasco de servicios sociales nos hemos juntado

transmitido también nuestras reflexiones con asociaciones como la que usted

médicos sin fronteras que desde luego desconocía todo lo que se había hecho en euskadi porque el estudio

es un estudio de carácter estatal en el que no tenían suficientes argumentos para poder detallar lo que en euskadi estábamos haciendo además también

más contagios en sus residencias habituales hemos hecho pcr a todas las personas tanto trabajadoras

residentes y con todo ello quiero trasladarle que desde el inicio de la pandemia hemos ido aprendiendo mucho y hemos ido poniendo encima de la mesa mucha serie de

la toma de decisiones requiere en cualquier actuación responsable analizar y a veces es muy complicada y en esta situación así lo ha sido pero desde luego lo hemos hecho desde la coordinación

la colaboración en euskadi como le decía antes parece que la situación se está estabilizando la mayoría de los casos positivos de las residencias se han trasladado a las unidades de referencia que teníamos ya establecidas unidades de referencia forales zadorra en vitoria gasteiz birjinetxe en bilbao y igurco unbe en loiu san josé

eso supone que las residencias de origen de los casos donde se iniciaron esos casos no hay corte de casos positivos es decir que están limpias y en estos momentos los casos positivos representan menos del dos por ciento de toda la población residenciada que como usted sabe son más de dieciséis mil personas

lo que le quiero decir es que la coordinación y la colaboración institucional y el modelo están dando resultados para atender a estas personas

señorías buenos días bien nos llamó me llamó la atención a mí y a más gente desde luego en la última visita del lehendakari

sánchez el presidente del gobierno uno de los temas que marcó la agenda

su oficialidad su representatividad

o sea no vemos en un momento como este la trascendentalidad

de esa cuestión de las selecciones deportivas en estos momentos pero al parecer ahí en esa reunión entre lehendakari y

sí sabemos que es una cuestión simbólica una cuestión recurrente pero

para exigencia de cuestiones fundamentales como se esa pues no le vimos desde luego la urgencia también

se ha concentrado en la cuestión de las selecciones deportivas vascas en la redacción de informes y visitar suiza

ya se sabe cómo se resuelve no que ya están claras para todo el mundo deportivo por eso

en esa reunión del lehendakari con el señor sánchez pues sobre fondos de recuperación europeo sobre

la exigencia de vacunas bueno que se tratase el tema de las selecciones deportivas

ante esa sorpresa yo le quiero preguntar qué actuaciones tiene previsto realizar el gobierno vasco en relación con la pretensión de oficialidad de las selecciones deportivas y desde luego incluidas en esa agenda del lehendakari a partir de esa reunión y a partir de la actividad
de su departamento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

y taquígrafos y no veo ningún motivo para que nadie quiera que se malogren

si cabe o no el reconocimiento de las federaciones vascas en sus respectivas federaciones internacionales el gobierno defiende que es una ambición legítima y defendible y serán las federaciones internacionales las que y decidirán si se ajustan o no a los reglamentos que tienen establecidos el gobierno vasco tiene la firme pretensión de internacionalizar la marca

es un elemento importante para ello por tanto compartimos con otras instituciones el objetivo

eventos deportivos internacionales del más alto nivel tenemos el firme compromiso de apoyar a los y las deportistas vascas de élite

en niveles de excelencia deportiva incluidos los juegos olímpicos y en la senda de la internacionalización de euskadi vamos a apoyar a las selecciones vascas que quieran ser reconocidas por los organismos internacionales correspondientes este compromiso está recogido en el programa de gobierno y es reflejo directo de la enmienda suscrita el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete

y el partido nacionalista vasco en esta misma cámara eskerrik asko

sí gracias presidenta sí muchas gracias por la contestación

pero es que es una cuestión que está resuelta es decir es que eso está resuelto vamos a ver el lehendakari entregó al

un informe sobre asuntos sin resolver y que figuraba la oficialidad de las selecciones deportivas pero ese tema

hay que distraer hay cosas muy importantes que hablar en esas reuniones no y sí nos gustaría saber si nos puede decir cuál es la respuesta del gobierno de españa a esta petición es decir un documento sobre cuestiones no resueltas donde se hacen este tipo de peticiones a ver qué es lo que

desde luego por el tribunal constitucional además asumida por el tema de las selecciones y la oficialidad de las selecciones deportivas asumida por el tramo deportivo

está establecida en el consejo superior de deportes en las asociaciones de deportistas profesionales

es decir solo es un conflicto o una cuestión no resuelta en el

y no en la realidad jurídica de la materia política deportiva siempre habrá oficialidad de las selecciones deportivas vascas cuando no haya federación española no o cuando no haya selección española eso está resuelto o sea que esa cuestión

tiene como objetivos principales la búsqueda de oportunidades para nuestras actividades industriales

la proyección internacional de nuestra cultura y la proyección internacional de nuestros deportistas clubes y federaciones el quince de diciembre de dos mil veinte dos años después de una decisión unánime de su asamblea la federación vasca de fútbol materializó

donde presentó la documentación requerida la federación de herri kirolak

la federación vasca de montaña es miembro de la federación internacional de montaña y la federación de boxeo es miembro de la federación mundial

la federación vasca de piragüismo participa en el campeonato del mundo de kayak surf como euskadi

en dos mil dieciocho la federación de surf presentó la solicitud oficial para incorporarse a la federación internacional y otro tanto hizo

acaba de hacerlo la federación vasca de fútbol me consta que estos mismos días la federación vasca de fútbol está en contacto con federaciones internacionales para que nuestra selección femenina pueda disputar algún partido internacional en las próximas fechas

el gobierno dará su apoyo a esta iniciativa y desde el gobierno seguiremos acompañando a las federaciones que decidan iniciar la ruta de su internacionalización

gracias señora presidenta señores consejeros ha podido comparecer la señora larrea por causa de fuerza mayor y me dirijo yo al señor consejero para plantear la pregunta

hecho públicas el fondo de todo es que las empresas de turismo pues eso lo dicen ellas y sus asociaciones están o están agonizantes y consideran que ha existido existe una ayuda insuficiente y tardía entre otras

todas desde marzo autobuses de eventos empresas establecimientos turísticos

otro tipo de eventos o de conferencias es decir

para el sector bueno ya se ha referido el señor consejero al principio de la mañana al plan y a bueno y a las medidas y a la orden

del referido plan diecisiete coma siete los incluidos en la orden de ayudas para el sostenimiento del sector turístico

que aparecen como claramente insuficientes entendemos esa cuestión que

en relación con la calificación de esas cantidades de esas magnitudes o de ese pequeño esfuerzo que en este momento se hace

pregunta que con el cierre de la hostelería además en las localidades que se encuentran en rojo o el resto de localidades que adoptan medidas la imposibilidad del desplazamiento y de la movilidad entre comunidades autónomas entre municipios es decir cómo valora ese dinero es decir

entender que es insuficiente y saber un poco la sostenibilidad de las medidas que el gobierno

inicial coyuntural eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko señora presidenta gracias señor barrio por la pregunta

el departamento de turismo comercio y consumo ha puesto en marcha un plan de resistencia para sectores de turismo hostelería y comercio

que hemos anunciado en este plan se sostenibilidad debemos tener en cuenta que las medidas que necesita

afectan a todas las instituciones administraciones y solo sumando recursos y coordinando medidas podemos ser más eficaces por ello hay que sumar aportaciones de otras instituciones por ejemplo las anulaciones o pagos fraccionados ayudas de las diputaciones

en marcha ayudas además de reducción de tasas bonificaciones tenemos la prestación extraordinaria por suspensión de actividad de los autónomos los erte

autoridad laboral como ya anunció la vicelehendakari idoia mendia los bonos al consumo y otras somos conscientes que los recursos son finitos y lo que tenemos que hacer en estas circunstancias es apoyar a los más vulnerables y hacerlo con el objetivo de sostener los empleos y la actividad hasta que podamos llegar a una

luchar por los empleos la actividad del turismo la hostelería

porque por parte de este departamento se cuenta en todo momento con el sector en la elaboración de los planes y las ayudas todos nuestros planes han sido hablados analizados y compartidos con el sector
porque desde el minuto uno lo dijimos queríamos aliados y seguiremos adoptando medidas en función de las circunstancias que creo que es la labor que tenemos que hacer muchas gracias eskerrik asko hurtado jauna

sí gracias gracias consejero por la respuesta pero vamos a ver son diecisiete coma siete millónes los de las ayudas que en este momento se ponen en marcha

para un entramado enorme es decir establecimientos de alojamiento turístico con sus epígrafes correspondientes y la diversidad

con también con su diversidad empresas turísticas de mediación hemos hablado de las agencias de viaje etcétera y sus amplios epígrafes también

actividades económicas empresas de transporte turístico empresas de turismo activo empresas profesionales organizadas de congresos

enorme y diecisiete coma siete millónes no es nada en relación con lo que busca esa orden que es

iba un poco más allá y me gustaría saber qué va a pasar es decir esto cómo se va a mantener en el tiempo porque ya se ha demostrado que en dos mil veinte ha habido una insatisfacción absoluta con las ayudas del gobierno vasco en relación con estos sectores que usted englobaba ahora en relación con la respuesta que ha dado

cómo se va a proyectar esto en dos mil veintiuno de momento hay unas ayudas

cómo se va a mantener en el tiempo tal y como se plantean estas ayudas

son un pequeño bálsamo no un tratamiento de cura y de recuperación es decir es un planteamiento puntual inmediato pero queremos saber la sostenibilidad de esto qué va a pasar cómo enfocan a la vista de lo aprendido
en dos mil veinte el dos mil veintiuno porque si no será terrible eskerrik asko barrio jauna hurtado jauna zurea sí gracias señora presidenta

no es su pregunta y no es el sector que usted lleva pero bueno yo

igual no me ha entendido o no me ha querido escuchar pero bueno igual si lo ponemos en boca de otros interlocutores mira le digo lo que dijo el señor carlos garrido presidente de la ceav de la confederación española de agencias de viajes

reconoció junto a eve la sociedad de representantes de la comunidad autónoma del país vasco

de una cuantía que si bien no son la salvación para las empresas sirven para dar un respiro y halo de esperanza para muchas

cuando hace referencia al país vasco es con diferencia la comunidad autónoma más generosa tanto el gobierno regional como las tres diputaciones

y yo tengo analizadas las ayudas de todas las comunidades autónomas y si quiere podemos ir hablando de unas y otras ya se lo dije a su compañera comunidades gobernadas por ustedes nos están llamando interesándose por este plan de sostenimiento del turismo porque insisto hemos sido pioneros y de forma contundente y no es una cuestión de sacar pecho o competencia con otras comunidades autónomas

por nuestro sector turístico sostenible y de calidad y entendíamos que teníamos que también ser los primeros en este apoyo este apoyo es importante está siendo reconocido por el sector y lo venimos diciendo siempre

pero yo creo que ahí hay que hacer ese trabajo de comparación y usted tiene acceso insisto a otras comunidades autónomas en las que hay cero euros de ayudas a estos sectores

como consejero de turismo comercio y consumo y como socialista

es y será el bienestar de las personas y en sostenimiento de sus empleos y le puedo asegurar que trabajamos cada día en ello y sobre todo en estos momentos de crisis para no dejar a nadie atrás

dos mil veintiuno hemos empezado con veintiuno millónes en este plan de sostenimiento del turismo

en definitiva lo que usted llama un sistema de apoyo sostenible a nuestros sectores

y modernización de los sectores del turismo y del comercio hablo de programas como hirigune de desarrollo de estrategias zonales de cooperación y dinamización

o por ejemplo sistemas de inteligencia de mercado tanto en turismo como en comercio con observatorios renovados que ahora queremos reforzar con la ayuda también de los fondos europeos y le puedo mencionar otros instrumentos como la red de colaboración público privada

son solo algunos de los ejemplos del trabajo que se ha hecho y se está haciendo para reforzar

con planes estratégicos estructurales y duraderos en el tiempo con medidas extraordinarias cuando las situaciones son extraordinarias como estamos viviendo ahora y sobre todo con la firme voluntad de seguir apoyando la resistencia
de los sectores hasta que llegue la recuperación económica muchas gracias eskerrik asko

señor hurtado creo que es importante que empecemos a hablar de indemnizaciones y no de ayudas

y lo décimos una vez más tenemos muy claro que la salud y la economía van de la mano que no hay economía sin salud pero de la misma forma reclamamos a la administración

argi eta garbi esaten zuen eta galdetzen zioten durante la pandemia las instituciones han hecho menos de lo que cabría esperar eta berak dio mucho menos

no es que hayan mentido que también no es que sigan mintiendo que también su gestión ha sido para perder la confianza en el ser humano la administración con la pandemia cerró y huyó y creo que es importante tener en consideración a una persona que ha estado treinta y cinco años como presidente de los hosteleros de bizkaia y creo que es

para tener en cuenta zuen mundua eta herritar eta

y las medidas son compartidas y todos convenimos que era el momento en noviembre de sacar unas ayudas en esa dirección ayudas directas

más del sesenta por ciento han sido aceptadas más de diecisiete millónes

y se empezaron a pagar tal y como nos comprometimos antes del treinta y uno de diciembre

y ahí vamos a introducir variables diferentes

usted lo que plantea son cuantías yo todavía no les he escuchado una idea concreta

insisto y las tengo aquí todas las ayudas de las comunidades autónomas con sus diferentes

hablar estamos hablando pero traigan ustedes ideas concretas ideas concretas

nosotros vamos a seguir trabajando con el sector y adecuando estas medidas y el reconocimiento que le

consideramos que la situación es muy difícil por ejemplo ahora tenemos municipios cerrados y otros no

pero como le digo primero hay que hacer una evaluación de las políticas públicas acabar esta orden de ayudas que estamos haciendo

y el sector del comercio dentro de los subsectores que están más afectados ese es nuestro trabajo y yo esto receptivo a escuchar ideas concretas y propuestas concretas

y también en las medidas de presupuestos o enmiendas podría haber hecho una elaboración mayor de esas propuestas pero bueno

a todos los grupos y como siempre hablando y discutiendo y compartiendo las medidas que vamos a tomar con el sector